arruabarrena jauna egun on denoi isiltasuna mesedez como saben un presupuesto aprobado permite a una institución desarrollar de forma

que contempla en su programa de gobierno permite cumplir nuestros compromisos con la ciudadanía garantizar el bienestar potenciar el desarrollo económico y el empleo

permite mantener y mejorar nuestro nivel de inversión en salud en educación en turismo en cultura en servicios sociales en justicia en vivienda

un presupuesto aprobado nos da la oportunidad de mantenernos en la vanguardia de la unión europea quince en igualdad en índices de bienestar y en innovación es cierto que el diseño del presupuesto requiere una intensa labor de análisis de necesidades de cuantificación

los compromisos que hemos adquirido para todos y todas es muy difícil decir no a determinadas cuestiones pero la gestión del no es también una parte importante de nuestra responsabilidad responsabilidad que este gobierno tiene para con una buena y rigurosa gestión de las cuentas públicas vascas

lo hemos venido demostrando el gobierno ha de ser consciente del marco económico presupuestario en el que se

ya que de lo contrario estaríamos hipotecando a euskadi elaborar un presupuesto requiere adaptarse a normativas que limitan en cierta medida nuestra capacidad de acción pero con las que debemos convivir para respetar el marco legal y competencial por ello

saber mirar a la cara a los retos que tenemos por delante y hacer una buena planificación presupuestaria para abordarlos

esas que nos permiten ver más allá de lo que tenemos justo delante dada nuestra situación de minoría parlamentaria necesitamos el apoyo de un grupo de la oposición

y aun no compartiendo el enfoque global deseen apostar por futuro me comprometo personalmente a realizar un esfuerzo por dar pasos que permitan

este gobierno como le decía trabaja el presente y apuesta por el futuro porque lo que seamos capaces de construir hoy será nuestra herencia para las personas que vienen

considero que tener este presupuesto aprobado es vital para el futuro de euskadi eskerrik asko eskerrik asko

onartuko digute erabakitzeko eskubidea esto me hace recordar un chiste bastante malo uno que dice no pues entonces de sexo ni hablamos no selección oficial no entonces de derecho

no es que tenga derecho lo cierto es que tiene el deber de decidir esta vez no le va a valer con decir que prefiere

si quiere estar con la mayoría de las gentes de este país o estar sentado en el palco de autoridades detrás de manolo el del bombo aunque

señora agirre este efecto positivo se consiguió con el mundial de basket

estos eventos fueron positivos para euskadi la eurocopa

entre ellas la española también puede ser positiva mal haríamos si no sabemos aprovechar esta oportunidad en su debido contexto mundu osoan

ayudas de lanbide en el mundo laboral gratuidad en el nivel be dos apoyo al conocimiento y uso del euskera entre la juventud ayuda al aprendizaje entre las

nuevas propuestas que vamos a desarrollar mostramos en todo caso nuestra disposición a añadir nuevas medidas para apoyar el aprendizaje del euskera especialmente
entre las personas que más necesiten ese apoyo por razones económicas o sociales eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

señora consejera estoy convencida de que usted y yo compartimos la opinión de que el turismo hace ya mucho mucho tiempo que dejó de ser una industria menor hoy el turismo vasco está aportando más de cien mil afiliaciones a la seguridad social y supone un diez por ciento del producto

y es verdad también que el turismo está creciendo está creciendo progresivamente está siendo constante ese crecimiento y también sostenido en el tiempo y

es importante en materia de turismo no solamente

sino también porque es nuestra tarjeta de presentación la tarjeta de presentación de euskadi en el exterior del territorio las líneas de trabajo

apoyando sus políticas desde el departamento de turismo comercio y consumo en el ámbito profesional del turismo están buscando fundamentalmente crear empleo de calidad están buscando fomentar el emprendizaje y también la adaptación del sector profesional retos tecnológicos pero esas líneas de actuación están siendo gestionadas a través también de una visión en el ámbito de la sostenibilidad en sus tres digamos principales líneas están ustedes gestionando programas con criterios de sostenibilidad medioambiental

económica y con criterios de sostenibilidad social nos parece importante que el objetivo entendemos que ese objetivo que están ustedes buscando fundamentalmente el que nuestras empresas turísticas las empresas turísticas vascas

los retos de futuro por eso los socialistas vascos queríamos conocer cuál es su balance de las medidas que están implantándose desde el departamento de turismo comercio
y consumo que usted lidera para mejorar la competitividad de las empresas turísticas vascas apoyando la innovación tecnológica eskerrik asko eskerrik asko

egun on guztioi efectivamente señoría consideramos que el sector del turismo vasco debe tener acceso a herramientas que impulsen su competitividad y el acceso a las nuevas tecnologías

es una línea cuyo objetivo es proporcionar a nuestras empresas soluciones tecnológicas para mejorar como decía la competitividad de sus negocios este programa posibilita soluciones por ejemplo de almacenamiento en nube gestión integral de negocio soluciones avanzadas basadas en procesos de big data

también ha impulsado aplicaciones para dispositivos móviles enfocados a actividades turísticas en dos mil diecinueve concretamente se han presentado ciento ochenta y siete

en una de mis comparecencias parlamentarias enuncié que para mejorar la gobernanza estábamos realizando evaluaciones independientes de nuestros programas departamentales

el programa ha conseguido aumentar significativamente el número de empresas turísticas de euskadi que utilizan tics y otras soluciones tecnológicas

y la eficiencia de los negocios turísticos también aumenta el número de empresas que mejoran la calidad de los servicios que ofrecen con una perspectiva de sostenibilidad medioambiental pero nuestra apuesta por la mejora de la competitividad y mejora de la innovación tecnológica en el sector del turismo vasco no se limita solo a programas como emet desde basquetour

este año además de los programas de mejora de la gestión sicted de la mejora de la digitalización del smart business de la mejora de la gestión ambiental de la ecoetiqueta y mejora de la eficiencia energética

el de la mejora de la accesibilidad y el del compromiso con el código ético del turismo de euskadi el programa de mejora de la accesibilidad tiene como objetivo formar de manera teórico práctica en pautas en atención a interacción con personas con necesidades diversas

y el programa de compromiso con el código ético del turismo en euskadi que presentaremos precisamente este lunes tiene por objeto el desarrollo de un código propio vasco basado en estándares

en la organización mundial del turismo para la mejora del sector y de sus actuaciones en cualquier caso finalizo destacando la preparación del sector

pero precisamente para mantener esta competitividad seguiremos trabajando desde el departamento

gracias señora presidenta señorías señores consejeros señor lehendakari muy buenos días yo le pregunto hoy sobre los trabajos para su nuevo estatus político que parece que ya

si nos anticipa algo de lo que podemos esperar en el futuro le haré alguna consideración general antes de que usted tenga la amabilidad de contestarme ayer ustedes tuvieron y aprovecharon la ocasión que brindó el partido socialista que vaya éxito el partido socialista

y también para renovar sus convicciones con su voto convicciones en el soberanismo la autarquía vasca la autodeterminación en el acercamiento a los presos en la liquidación de la reforma laboral en fin es lo que vivimos nosotros también ayer aquí

por lo tanto pues yo la capacidad suya de retorcer los conceptos no tiene límite y lo vamos viendo en españa

el progreso lo encarna podemos aunque donde se aplican sus recetas pues no parece que nadie progrese demasiado y ayer descubrimos y esto es nuevo

el nacionalismo la cara del nacionalismo moderado y yo le pregunto también
si la democracia es bildu y el progreso es podemos me puede usted explicar señor lehendakari qué es la moderación eskerrik asko alonso jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor alonso tiene usted una virtud suele empezar bien de manera interesante las intervenciones luego las trufa con unos chascarrillos que desperdicia usted lo que es

el debate que pudiéramos tener usted me pregunta por el trabajo de la comisión de expertos para el texto articulado del nuevo estatus no por otra cosa

y yo le respondo a pesar de que usted haya hecho un ejercicio de anticipación yo le respondo que hasta el lunes yo desconozco lo que la comisión de expertos presentará

nuestro mi reconocimiento y agradecimiento a las personas que han trabajado o estén trabajando todavía en la comisión de expertos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

esfuerzos para que usted no se aburra cuando yo le interpelo pero me ha dejado muy preocupado

hasta la última línea claro que lo conozco es más creo que forma parte de mis obligaciones conocerlo

es que estoy muy inquieto lo conoce todo el mundo en la cámara menos usted sale publicado en los medios de comunicación lo leemos en los periódicos se habla de ese asunto todo el mundo habla del tema y el único que no lo conoce es usted no sé yo

quiero pensar que no mire yo le voy a explicar entonces lo que ha pasado ahí y qué es lo que ha salido de ahí y qué es lo que el lunes

hay una cosa que anda como un pato vuela como un pato nada como un pato y hace cuacua

a los expertos o a su compañero de partido que está como experto designado ahí

el mismo resultado lo que pasa es que ahora se llama concierto político y antes no sé si era un estado asociado o cómo lo llamaban ustedes

se liquida cualquier posibilidad de competencia de españa en el de país vasco hay nacionales vascos

lo apoyó también el señor madrazo si se acuerda usted y lleva al mismo callejón sin salida que llevaba el plan ibarretxe y puede provocar la misma división

señor urkullu y a mí me preocupa profundamente porque es lo que le ha salido a usted lo mismo

aseguro que nosotros vamos a ejercer nuestra capacidad donde podemos ejercerla para que eso no vaya a ningún lado tenga usted la absoluta seguridad que de manera muy moderada lo haremos pero me preocupa la deriva que está usted teniendo y le voy a decir una cosa con todo el respeto y sin que se ofenda estamos empezando a echar de menos al señor ibarretxe porque el señor ibarretxe al menos no nos engañaba

entre el original y la copia no sé dónde se quedará usted señor

en todo caso sí le quiero decir que la comisión de expertos ha sido designada por este parlamento también por su grupo y responde a un proceso institucional más amplio y no ha sido designada por el lehendakari el objetivo de la ponencia señor alonso es llegar actualización y profundización del autogobierno vasco con el máximo consenso posible manifestado así en reiteradas ocasiones también en la tarde de ayer y este proceso ni empezó ni termina con esta comisión señor alonso

de autogobierno no es la ponencia del derecho a decidir es la ponencia de autogobierno la que tendrá que desarrollar también lo que presente el lunes la comisión de expertos cuando estamos a punto de conocer el fruto de su trabajo y yo no lo conozco señor alonso podemos afirmar que

gracias a su trabajo tendremos una primera aproximación a un texto articulado en el que se han identificado ámbitos de amplio consenso señor alonso y también algunos disensos

la seriedad el rigor el respeto a las diferentes posiciones y la búsqueda de mecanismos para acercar posturas y esta metodología ha constituido una buena práctica al menos hasta que en estas dos últimas semanas algunas formaciones políticas señor alonso han tratado de condicionar ese trabajo desde fuera

considero que el resultado del trabajo de la comisión será positivo

ofrece una base para actualizar y profundizar el autogobierno vasco por ello expreso nuevamente mi reconocimiento y mi agradecimiento a la labor de la comisión de expertos y ahora se debe retomar cuando se presente las conclusiones o el texto que presente la comisión de expertos se deberá retomar en este parlamento yo planteo

realismo más responsabilidad planteo desarmar las palabras y aplicar los criterios que han seguido la comisión

es un modelo de referencia útil para responder a la tarea que tenemos encomendada ofrecer un marco de convivencia renovado en esto consiste

sigamos construyendo sobre la base de los consensos ya alcanzados para buscar acuerdos en los disensos existentes beraz

pero el reto y la oportunidad es avanzar en más y mejor autogobierno que supone más bienestar nos corresponde diseñar el marco de convivencia de los próximos años para nuestra sociedad teniendo en cuenta su pluralidad su historia y sus

usted señora tapia tenía que ser la primera de la clase y casi tres cuartas partes del presupuesto climático

pero claro cuando nos lo han mostrado pues han aparecido cosas muy raras y se ve que usted ha estado pinta que te pinta y ha pintado de verde lo que efectivamente era verde

y usted se pasó de frenada se pasó de frenada y nosotros y nosotras le pillamos y cuando le preguntamos usted para salir del paso nos mintió

no tengo tiempo de desmontarlo todo pero me gustaría subrayar varias cuestiones lo primero la falta de rigor

pero sobre las partidas concretas que usted ha anunciado hay mucho que decir porque

lo que parece y lo que no es y ha hecho un forzamiento para incluirlo todo pero claro en ese ejercicio de forzar las cosas lo que usted a mi parecer ha mostrado un desconocimiento bastante preocupante de algunas cuestiones clave de la lucha contra el cambio climático y en ellas me quiero centrar

renove planarena zuk sartu duzu klima larrialdi partidetan yo le dije en comisión que opinábamos

no se podía considerar como parte de la política climática y usted me dijo oiga señor otero

yo le estoy dando datos y le digo que el renove sí que el renove es parte de la lucha contra el cambio climático y claro ese día yo no tenía tiempo pero ahora tengo un poco más y le voy a dar unos datos según

las emisiones medias de vehículos a sustituir y nuevos el promedio de kilómetros de su vida útil todo basado en estadísticas oficiales como se puede imaginar tenemos que

ahorramos por kilómetro recorrido con los coches nuevos cincuenta gramos de ce o dos eso significa que la vida útil del vehículo va a ahorrar ocho coma cinco toneladas de ce o dos y eso significa que si el plan renove se extiende como el anterior

de ce o dos pero esto tiene una cara b una cara b que a usted no le gusta contar

es decir para tener la foto completa tenemos que contar los ahorros derivados por el tubo de escape evidentemente pero también las emisiones que suponen poner esos vehículos nuevos en la carretera vale y yo le he hecho una estimación también basada en la mejor ciencia disponible le puedo pasar las referencias

en renovación de maquinaria etcétera etcétera cuesta doce coma cuatro toneladas para un plan renove de dos mil vehículos son veinticuatro mil ochocientos toneladas es decir que el plan renove para dos mil vehículos gasolina gasoil diesel en promedio supone un aumento de emisiones

no se puede considerar el plan renove gasolina gasoil como lucha contra el cambio climático

como ayuda al consumidor regresiva porque no tiene criterios de renta como propaganda electoral si lo hace en un buen momento incluso le admito que pueda

pero nunca nunca se puede meter el plan renove como lucha contra el cambio climático a no ser que quieran

y la otra cuestión y quiero hablar de la joya de la corona el tema del tren de alta velocidad y la variante sur ferroviaria

porque si sacamos esta partida se nos cae el veinte por ciento de los presupuestos climáticos y yo le digo que

por los que usted ustedes no pueden meter el tren de alta velocidad como una inversión o

la primera es la controversia sobre la análisis de ciclo de vida que le acabo de explicar no vale como el renove hablar de que es eléctrico y ya está emite menos porque usted sabe

y hay publicado un estudio como usted sabe que estudia que el ahorro neto en emisiones en el ciclo completo de vida así que como inversión climática como mínimo lo vamos a dejar cuestionado imaginemos que usted obvia esto

tiene un segundo problema porque ustedes nos han repetido todos por activa y por pasiva que el tren de alta velocidad es presupuestariamente

que es inversión del estado pues si es presupuestariamente neutro

es climáticamente neutro porque si lo incluyen aquí ustedes tienen un problema de doble contabilidad porque si el tav es beneficioso

los dos así que eso es una gran trampa pero hay más

tiene un tercer problema porque si el tren de alta velocidad es climáticamente beneficioso y lo cuentan como inversión propia

resulta que el esfuerzo presupuestario total en políticas climáticas no aumenta sino que cae porque en esta misma legislatura ha habido un presupuesto aprobado el dos mil diecisiete en el que había trescientos cincuenta y cinco millónes de euros para el tav y yo le he hecho un barrido aplicando sus criterios climáticos y me sale evidentemente que en el dos mil diecisiete el presupuesto climático era muchísimo mayor en el dos mil diecinueve así que la inversión del clima si usted defiende el tren de alta velocidad como gasto climático y propio

el año de los presupuestos climáticos estas partidas no están aumentando sino que están decreciendo pero sobre todo hay un problema mayor

que es el mayor de todos que es en que en la comisión de presupuestos yo

le pregunté el tren de alta velocidad está incluido en los presupuestos climáticos y usted me dijo no no

yo a mí no me cuadraban las cuentas porque de dónde iban a salir doscientos cincuenta y seis millónes de euros en movilidad sostenible dentro del departamento de tapia para los presupuestos climáticos y efectivamente

así que usted mintió mintió en sede parlamentaria y por ahí entiendo que no podemos pasar ninguno así que yo creo que solo tiene una salida ahora reconocer que se equivocó y eso podría haber

pero desde luego en cualquier caso yo le exijo aquí una rectificación porque si no creo que tenemos que hablar de palabras mayores

ciento setenta y seis coma uno millónes euros y decíamos

es verdad créditos de gestión noventa y cinco coma doscientos noventa y siete millónes de euros que se descuentan del cupo por tanto

completos del gobierno deben estar ahí y si décimos son créditos de gestión parte del cupo hablábamos de variante sur ferroviaria del topo del tranvía y de mejoras en nuestras líneas y también hablábamos de autobuses eléctricos inteligentes hablábamos de políticas en gestión de suelo hablábamos de saneamiento y ordenación en láminas de agua

de reparación de diques de abrigo también en nuestros puertos y de

detalladas pero vamos a lo que usted me preguntaba en dos elementos muy concretos

ser riguroso y ser serio voy a procurar ser rigurosa y ser seria si hablamos del tren de alta velocidad su aportación a la lucha contra el cambio climático no es un debate nuevo es un debate ya bastante antiguo y no he querido remontarme en exceso en el tiempo pero sí hay un artículo científico de un catedrático

de suecia que lo he elegido porque es el más citado en todas las publicaciones

en el año dos mil once ya en la que él hace un análisis como a usted le gusta por cierto y habla de cuáles el papel de las infraestructuras de alta velocidad en la mitigación en la lucha contra el cambio

desde el concepto de la perspectiva del ciclo de todo el ciclo de vida de todo el ciclo de vida como a usted le gusta y habla de una línea concreta en suecia entre y

bueno y él lo que viene a decir trata los dos temas cuando la infraestructura está en funcionamiento

cuando se está construyendo la infraestructura y viene a concluir que las infraestructuras de alta velocidad tanto durante su construcción

como la aportación que hacen a posteriori salen positivas en cuanto a su aportación a la lucha contra el cambio climático no lo digo yo hay otro estudio de un

en septiembre de dos mil diecinueve es decir ayer en la que dice que para

las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad es decir le dice europa algo así lo he traducido

pero que no se consideran los efectos sociales las reducciones de ce o dos o el desarrollo territorial que ello supone y que ante la crisis que se presenta europa debe montar lo dice así en el tren de alta velocidad antes de que abandone la estación no contentos con eso la propia unión europea encarga la comisión europea encarga a la universidad de

que pretende reconocer y conocer la contribución de cada modo de transporte en políticas contra el cambio climático como está en castellano lo voy a leer literal

sugiere que los responsables políticos de la unión europea deben actuar ahora para evitar daños la limpieza del transporte con un desplazamiento al ferrocarril es una solución obvia

un problema importante según este estudio esto debe ser respaldado por una inversión sólida tanto a través del mecanismo

como de recursos nacionales en infraestructuras ferroviarias nuevas y mejoradas incluidos los corredores europeos

fronterizas de alta velocidad con alto valor añadido en la unión europea es decir

lo dice el estudio que se ha entregado a la unión europea y continúa después y para que no se me acabe el tiempo dice que el ferrocarril el modo de transporte terrestre más eficiente desde el punto de vista energético podría desempeñar plenamente su papel como eje de transporte en un sistema multimodal

no solo el tren de alta velocidad sino todas las mejoras que estamos haciendo desde el punto de vista ferroviario pueden así ser consideradas me preguntaba por la electricidad y no me voy a olvidar la electricidad se compra se lo dicho en más de una ocasión de forma centralizada y lo acabamos de aprobar por tanto está donde tiene que estar no me quiero olvidar del tema del tema de la subvención de los vehículos renove

teniendo en cuenta como usted dice toda la visión general y la visión a lo largo de la vida desde luego si la flota

que dice si la flota diesel española la española completa anterior a dos mil nueve

las emisiones de ce o dos en las ciudades bajarían un seis por ciento pero el veintidós por ciento en las carreteras no ciudades

politika industrial finkatuzera doana de veinticinco

ese es el verdadero hecho diferencial de los presupuestos del departamento de usted señora tapia y no la política climática

y no vale para subrayar la política climática subrayar

y se ve perfectamente en el renove usted nos ha metido como partida climática el acondicionamiento de la urbanización de activos de sidenor

errotaberri de zarautz usted nos ha metido como partida climática los intereses de sendotu

y usted nos ha metido como política climática y de sostenibilidad la estabilización de la ladera del polígono de aspe con tres coma tres millónes de euros sostenibilidad qué es sostener la ladera o sea eso es sostenibilidad es que se ha pasado de frenada señora tapia se ha pasado de frenada ha hinchado completamente artificialmente lo que no era verde y le ha salido lo que le ha salido

un churro en resumen en resumen ustedes tienen un problema

y al resto de la oposición le podrán decir misa incluso conseguirá que alguno diga que estos

y podrá salir en la tele en la radio y donde quiera señora tapia

pero hay alguien a quien no le van a poder engañar que es al propio clima porque a ese le da igual

y las emisiones en esta legislatura más allá de lo que ustedes nos quieren vender y que todas sus políticas son

todo lo que ustedes quieran las emisiones están aumentando están aumentando y un montón no están disminuyendo ayer el parlamento europeo declaró la emergencia climática como sabrán y dijeron que

zer esan dion garraio komisaria izango denari de acuerdo con la nueva

la nueva comisaria de transportes tendrá como guía de actuaciones bueno pues tendrá un vicepresidente ejecutivo que es frans timmermans que usted lo conoce muy bien para coordinar el trabajo en el pacto verde europeo y en la carta que de alguna forma recoge la misión los objetivos que tiene que cumplir la comisaria la presidenta le habla a la comisaria de transportes

y le dice también que tiene que abordar la modernización de los sistemas de transporte a través de una movilidad conectada y automatizada basada en la innovación y que además tenemos que completar los enlaces de infraestructura que faltan

sailburuok legebiltzarkideok denoi egun on señora tapia cuando nos proponemos organizar algo

cuando lo que nos proponemos es organizar un espacio público en este caso el puerto y la ría de plencia obviamente aplicando ese criterio

pero además dejarlo de forma que lo puedan seguir utilizando todos y todas los usuarios y usuarias y que lo hagan con más comodidad que lo hacían anteriormente y en esta cuestión de la reordenación del puerto y ría de plencia ustedes algo han debido de hacer mal porque en un pueblo de

por lo que han hecho en el puerto eta nire galdera da

yo le voy a dar las soluciones que plantearía nuestro grupo y me gustaría contrastarlas con usted en esta interpelación sobre cómo pueden arreglar el desaguisado que están montando

le he dicho que entre los errores graves que han cometido el primero es el de haberlo hecho sin participación y sin información pública entonces por lo tanto yo creo que la primera respuesta que habría que dar es retirar el proyecto tal y como lo hemos pedido muchos grupos de la oposición la segunda cuestión

es decir en los pantalanes que han planteado han hecho unos cálculos considerando el efecto del viento pero no han considerado el efecto de las fuertes corrientes de mareas

de las avenidas que se pueden producir en la ría de plentzia que como usted sabe es

de la cuenca del butrón de casi doscientos cincuenta kilómetros cuadrados

no se puede navegar y que cuando la marea es máxima la velocidad de la corriente es tan fuerte que muy probablemente los

pantalanes que han planteado además como le he dicho antes

espacios públicos es decir cuando ustedes han planteado el proyecto de poner nuevos pantalanes han cegado rampas de acceso y han cegado escaleras que eran de acceso público es decir están ustedes privatizando un espacio común en favor de unos privados y además no han evaluado el impacto que tiene el impacto ambiental el impacto paisajístico y el impacto cultural que tiene este proyecto

pero es que además ustedes han planteado un proyecto en el que no va a haber sitio para todos y todas los usuarios estos pantalanes que han planteado ustedes

es de cuatrocientos amarres contando con los que ya existen ahora mismo en el puerto y saben ustedes que la demanda está por encima de los cuatrocientos setenta

eso qué significa que teniendo en cuenta que cuando ustedes pongan los nuevos pantalanes va a poder solicitar amarres gente que no vive ni en plentzia ni en barrika es decir gente que va a traer sus barcos de getxo de bilbao o de otros sitios más lejos

van a tener que salir de la ría van a tener que salir de la ría y esto es especialmente importante porque

se quedaron más de ciento veinte embarcaciones fuera pero se les permitió seguir atracando en la ría con boyas ahora si eso sucede si se quedan fuera van a tener que sacar

en primer lugar que nos diga por qué han cometido tantos errores y todos juntos y en segundo lugar pues qué van a hacer para solucionar esta cuestión y de alguna manera

malestar en el pueblo del que ya han creado hasta el día de hoy eskerrik asko

voy a tratar de explicar de dónde nace este proyecto dónde nos encontramos en este momento

hay muchísimas embarcaciones que están obstaculizando en este momento el normal tránsito a través del canal de navegación

un riesgo para la seguridad debido precisamente a la falta de ordenación a la ausencia de control documental y a la inexistencia de un mínimo cumplimiento

en este sentido partiendo de ahí nos propusimos ordenar y ante esta situación analizar qué es lo que estaba ocurriendo y hacer un primer análisis del censo de embarcaciones que se encontraban en los diferentes ámbitos del municipio de plentzia de ese análisis

que había cuatrocientos treinta y tres embarcaciones doscientos cincuenta y nueve matriculadas doscientos cuarenta y siete identificadas y doce sin identificar

ciento veinte sin matrícula visible y cincuenta y cuatro aparentemente

bueno partiendo de esos datos que creo que son importantes se propuso una primera ordenación un proyecto de ordenación y un proyecto de ordenación utilizando pantalanes que se presentó en febrero de dos mil diecinueve y que se trabajó con el propio municipio y del cual resultarán trescientos noventa plazas de amarre disponibles para el puerto de plentzia ciento ochenta y dos pantalanes desplazados a lo largo de la ría

y doscientos ocho en el puerto interior donde se encuentran ahora

ganaríamos de ciento sesenta y cinco a doscientos ocho plazas bueno cómo se iba a hacer el reparto bueno pues también es un procedimiento habitual como se realiza en cualquier otro puerto gestionado

y me extraña que usted me diga que vamos a privatizar cuando realmente lo que se hace es justo lo contrario

en manos de unos amarristas que lo que proponemos es ayudar y colaborar y que sea ekp un

que aprobamos la ley de puertos y que se está convirtiendo en un ente público de derecho privado quien gestione todas esas plazas y lo haga exactamente igual que se hace en el resto de los puertos gestionados por ekp es decir por tanto no hay

eta esan zuen eta esan zuen la asociación de usuarios de proa avala al proyecto de reordenación de la ría de plentzia

nahasterik nahi eta aipatzen zuen el gobierno municipal valora de manera positiva el proyecto puesto que da respuesta a una reivindicación

baina ez da hor gelditzen baita ere aipatzen du se trata de un proyecto bueno para plentzia puesto que daría respuesta a esa reivindicación

y soluciona los actuales problemas de navegación y las dificultades de acceso a las embarcaciones

el gobierno vasco nos ha comunicado que el proyecto ofrece a día de hoy margen suficiente para poder incorporar soluciones adaptadas a las necesidades de los vecinos y vecinas

que queremos recopilar y eso sin duda es una muy buena noticia eta baita ere esaten zuen beraiek hasiko dutela prozesu bat iniciará una breve ronda de contactos con agentes sociales del municipio para recabar sus demandas y trasladarlas al gobierno vasco para su estudio y posible incorporación

es evidente es evidente que se puede hacer de otra manera también es evidente ustedes ni en cuanto a los impactos ni en cuanto a las soluciones técnicas que han dado han acertado hay soluciones mucho menos impactantes hay soluciones que permitirían incorporar

y que incluso requerirían menos inversión solo tienen que ir a puertos de otros sitios de rías

vayan a ver a bretaña vayan a ver a cornualles y encontrarán soluciones técnicamente factibles y que encima no provocan no provocan un cierre o una privatización de las márgenes de esa ría usted ha dicho que han obtenido el aval del ayuntamiento y que han tenido también

interesante porque ustedes han conseguido ese aval después de haber ido y permítame la expresión a comerle la oreja a la asociación de amarristas

a la cual no pudieron ir ni siquiera todos los asociados de esa asociación porque incluso porque incluso la propia asociación no sabe ni cuantos asociados tiene entonces

debería darnos una idea de hasta qué punto la participación que ustedes están reclamando

digamos defendiendo como propia no es tal pero a mí me gustaría porque usted se ha referido también a la ley de puertos ha dicho vamos a atender ahora ahora vamos a atender las demandas de la gente cuando se tramitó la ley de puertos la señora otamendi se

el partido nacionalista vasco y el partido socialista introdujeron una enmienda incrementando las funciones metiendo todas las funciones que tenía que iba a tener el departamento en este caso de desarrollo económico en materias de política portuaria

todas las competencias y todas las funciones planificación de las actuaciones

gestión construcción explotación conservación protección

absolutamente todas las competencias qué sucede que cuando esas competencias se ponen en marcha y además

absoluta absoluta tiene que tener en cuenta dónde está actuando en qué

son espacios que se le están hurtando a un pueblo que se le están hurtando a un pueblo para ponerlos en manos de otra administración que en este caso es el gobierno vasco

porque de alguna manera se está dando toda la potestad de organizar ese espacio a un ente que no es del pueblo entonces

para que los órganos consultivos y de participación donde se juntaban el gobierno y las administraciones locales fueran organismos interinstitucionales y con capacidad

de decisión vinculante ustedes se opusieron

que en esos órganos hubiera una representación paritaria con decisiones vinculantes

con voz pero sin voto de la sociedad civil de la sociedad civil

lo que es un puerto para un pueblo vasco costero no es solo

un puerto en cualquier pueblo de euskadi es el centro de la vida social es el símbolo cultural del pueblo es un espacio recreativo e incluso

no se puede entrar como un elefante en una cacharrería a organizar algo que el pueblo por mucho que la ley de puertos de dos mil dieciocho haya cambiado lo siguen considerando que es el pueblo y no puede ir el gobierno a hacer en ese espacio que el pueblo considera suyo a hacer lo que le da la gana y como le da la gana por lo tanto

que por respeto al pueblo de plencia ustedes retiren este proyecto y lo rehagan con su participación

tal como señalaban los datos del módulo de la epds los datos apuntan a un proceso de polarización social en euskadi tienden a crecer tanto las situaciones de integración

de un agravamiento de su situación o de una mayor acumulación de carencias baina epds txostenean ohartarazi genuen bezala bada txosten honek erakusten duen argazkian

que dentro de la sociedad integrada se está produciendo una quiebra en la base hablamos de un grupo muy amplio de personas el más grande desde que se analizan los datos según la encuesta del epds que se encuentra en una situación de inseguridad

al que les afecta cualquier imprevisto tienen dificultades para afrontado y serán las primeras en notar los síntomas del proceso

personas al límite con riesgo de caer y sin red estas personas representa el dieciséis coma cuatro por ciento de la población y ha crecido y mucho en los últimos cinco años

mucho mayor al del conjunto del estado español y una realidad que matiza ese dato inicial del ochenta y cinco por ciento de sociedad incluida porque revela cómo están viviendo las personas la recuperación

con una gran dosis de precariedad la precariedad vital se instala señora artolazabal en nuestra sociedad esta es la nueva realidad

tasa altuagatik tendrá que reconocer cuanto menos señora artolazabal que este empleo no parece ser la mejor política social contraseña incorrecta

decía que el gobierno de urkullu está pegado a un discurso triunfalista

importan más las creencias y sostenerlas a base de repetición que operar a partir de datos e información real proveniente de fuentes muy solventes incluso de sus propias estadísticas oficiales

no no hay apuestas estratégicas en el sentido de esas nuevas realidades que nos marcan ni las encuestas de la epds ni foessa ni nada estos presupuestos no son ni verdes ni morados

más sociales todos esos datos toda esa nueva realidad que nos viene de manera aumentada no han sido capaces de modificar ni lo más mínimo el presupuesto de este año ni para reforzarlo ni para

inserción y tampoco lo hay en materia de empleo no parece que esas jornadas organizadas en el kursaal hayan sido ni siquiera

señora kortajarena en primer lugar yo quería subrayarle que compartimos

los propios centros vascos más especializados en estas problemáticas analizan la cada vez mayor complejidad de la exclusión social y es que para estos especialistas pobreza y exclusión no siempre van de la mano según sus estudios el cuatro coma seis por ciento de la población vasca es pobre pero no excluida y el cinco coma nueve por ciento

siguiendo palabras de estos especialistas el concepto de exclusión ha dejado de dividir entre arriba y abajo

y el creciente envejecimiento de la población está trayendo en toda europa nuevas formas de exclusión luchar contra la soledad entre las personas mayores es una de nuestras prioridades

vinculadas al envejecimiento y a la soledad producida por los cambios sociales y familiares

el porcentaje como usted ha dicho de la población en inclusión plena en euskadi asciende al ochenta y cinco por ciento

ehuneko hamazazpitik ehuneko hamabostera jaitsi dira el porcentaje de población

y la inclusión ha mejorado notablemente entre los años dos mil trece y dos mil dieciocho los porcentajes de integración plena han crecido casi veinte puntos en estos últimos años no estoy satisfecha pero la realidad es que nuestras tasas de desigualdad son reducidas y se han ido reduciendo entre dos mil trece y dos mil dieciocho así la tasa de inclusión precaria ha bajado del cuarenta y cuatro al veintiocho por ciento

las tasas de exclusión social en euskadi son las más reducidas del estado remitiéndome a los últimos datos conocidos la pobreza extrema en euskadi

a cincuenta y uno personas de cada mil mientras que en europa atrapa a sesenta

estos son los factores que más condicionan la inclusión y el avance y el avance que le digo es notable

una de las hipótesis que barajamos para entender esta compleja situación

recientemente envejecida y qué hace el gobierno vasco frente a esta complejidad

intervienen muy por encima del resto de todas las comunidades autónomas en protección social el gasto social representa el ciento treinta y cinco por ciento sobre el estado esto es un treinta y cinco por ciento más que la media en euskadi se invierte el doble de euros por persona que en el estado español y este dato figura invariablemente año tras año en todo tipo de informes independientes el gobierno además

ante situaciones complejas múltiples palancas de actuación desde el acuerdo interinstitucional

que ya el ochenta por ciento de las iniciativas que están incluidas en este plan están en funcionamiento

con una actitud de mejora continua sabemos que aunque en niveles más bajos que la unión europea o en españa la desigualdad

y según el índice gini estamos cuatro puntos por debajo con respecto a la unión y casi siete puntos por debajo respecto a españa pero no estamos satisfechos con estos datos

crece mucho la integración plena pero no hemos logrado todos nuestros objetivos

y una exclusión cronificada la consideración de la pobreza como fenómeno relativo

crezca si crecen los ingresos medios y en la media de la pobreza se establece en función

si el crecimiento es desigual el umbral de pobreza social puede crecer aunque desde un punto de vista de percepción relativa y sí la pobreza crece

del incremento de los ingresos medios y permítame reforzar algunas de las principales conclusiones que vienen recogidas en este informe la foto que nos queda

se encuentra en situación de inclusión según el informe los niveles de integración social han mejorado entre el dos mil trece y el dos mil dieciocho considerablemente y en dos mil trece el grupo mayoritario de la sociedad vasca era el de integración precaria un cuarenta y cinco por ciento de la población en aquella fecha y en dos mil dieciocho el grupo mayoritario

la proporción de población en situación de integración plena en dos mil dieciocho supera por tanto casi en veinte puntos la existente hace cinco años

en situación de integración plena nos preocupa que las tasas globales de exclusión apenas se reducen y que gana peso la exclusión severa

en primer lugar durante el periodo posterior a la crisis euskadi desempeña un papel de territorio refugio para mucha población

esto se traduce de forma particular en una inmigración que resulta comparativamente muy superior en términos relativos a la observada en el resto del estado y en segundo lugar durante el mencionado periodo se va reduciendo de forma notable el volumen de personas sin capacidad de acceder a la emancipación

en situación más precaria en términos de integración económica y social también este informe constata que el envejecimiento de la población

y puede que ese mayor gasto social haya llegado a un nivel donde el problema no sea el volumen del mismo sino la forma en que se distribuye

y perfiles poblacionales en nuestra opinión la población de la nueva ley para la gestión de la renta de garantía de ingresos puede contribuir a mejorar esta distribución la reforma de la renta de garantía de ingresos debe contribuir a mejorar la situación de las familias con hijos o hijas así como la de las personas con acceso a remuneraciones por trabajo

el riesgo de exclusión social es más elevado entre los hogares sustentados por personas jóvenes mujeres inmigrantes y personas desempleadas así como entre los hogares compuestos por familias numerosas y monoparentales y en resumen le podría decir que partimos de una buena situación

pero nos preocupa por un lado la cronificación o el estancamiento de las situaciones de exclusión más severa y por otro lado la fragilidad de la red del colectivo

y en este proyecto de presupuestos que nosotros hemos presentado para el año dos mil veinte hemos incluido herramientas que nos van a permitir afrontar estos retos mila esker

no sé si compartimos esa visión que decía lo que sí compartimos es lectura porque usted también ha traído aquí datos del informe

si yo aquí he traído una visión simplista la misma que ha traído usted me parece bastante grave decir que después de un análisis tan solvente como el que nos plantea foesa

propia usted me diga que esta es una visión simplista yo me reafirmo y usted se debería reafirmar después de lo que nos ha leído aquí en las consecuencias del informe

tienden a crecer tanto las situaciones de integración plena como las de exclusión severa

del incremento del número y del peso relativo afectado por las situaciones de exclusión severa que viene acompañado de un agravamiento de su situación y de una mayor acumulación de carencias y esta es la nueva realidad que tenemos acompasada con todos esos detalles que usted ha dado aquí sobre el envejecimiento de la población y otra serie de detalles que vienen recogidos en el informe creo que el relato el relato construido por este gobierno viene desmontado ya

yo aquí no quería entrar en una guerra de datos yo lo que quiero hoy es mirar a futuro y por eso le preguntaba cuáles cuáles eran los planes que usted tiene para futuro qué plantean cuando usted está reconociendo aquí aunque tiende a ese negacionismo cuando está

que euskadi tiene una realidad diferente y que de cara a futuro tiene una serie de elementos que son cuanto menos preocupantes y a los que hay que dar una respuesta y no sirve con que reafirmemos o subrayemos este tema del ochenta y cinco por ciento de la integración tan importante es la situación de las personas integradas

y esta es una preocupación que no es nueva para nosotros begira nik orain dela bi urte nire lehenengo interpelazioa egin nion urkullu lehendakariari

y además así hemos debatido en numerosas ocasiones en esta misma

yo sí que le quisiera decir que el esfuerzo que el gobierno está haciendo para que la situación de las personas que vivimos en este país

de esta legislatura lo hemos venido poniendo encima de la mesa hemos sido implementando políticas con recursos y hemos visto los resultados que se están dando y los resultados señora kortajarena son que en este momento el ochenta y cinco por ciento

de las personas que vivimos en euskadi estamos en una situación de inclusión pero también es verdad que tenemos un problema y eso se lo reconocido en mi primera intervención y eso creo que

es verdad que desde las políticas sociales únicamente no podemos atender todas estas iniciativas y por tanto en ese plan cuarto de inclusión con la colaboración de todos los departamentos hemos ido poniendo encima de la mesa diferentes iniciativas

esas iniciativas están dando sus resultados aunque sí que es verdad que nos preocupan situaciones que se están cronificando como le decía

y también las medidas que hemos implementado disponemos en este momento como le decía una mirada multidimensional que ya

analizando diagnosticando estableciendo esas herramientas para poder ponerlas en marcha y las estamos poniendo

es el empleo creo que tenemos cosas que hacer en el empleo y creo

a gente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad a parados de larga duración

porque además esta semana conocíamos que se había producido el récord de

y esa política de empleo que seguro que es mejorable sí que está dando resultados importantes

pero seguimos teniendo que trabajar y cuando hablamos de inclusión

y estas actuaciones inciden en todos aquellos ámbitos de la vida cotidiana que puedan imposibilitar el ejercicio del derecho al trabajo a la educación a la formación a la cultura a la salud o a una vivienda digna no y a través del desarrollo de actuaciones previstas en el mismo se espera reducir la

y en estos momentos estamos haciendo numerosas iniciativas ya les comenté en la presentación del proyecto de presupuestos algunas de las nuevas líneas de actuación se van a reforzar las políticas de inserción laboral destinadas a las personas que todavía reciban la prestación de rgi se están haciendo diversos programas

apostando por políticas innovadoras que les permitan tener esas oportunidades y en este área destaca una partida de uno coma ocho millónes de euros destinada a financiar el seguimiento y acompañamiento de personas que se encuentran en situación prelaboral

también queremos ayudar a superar estas dificultades de empleabilidad que tienen para el ejercicio dos mil veinte prevemos también una apuesta decidida en el ámbito de la discapacidad para ello vamos a aumentar la cuantía destinada a los centros especiales de empleo a las unidades de apoyo para el mantenimiento y creación de más puestos de trabajo

y vamos a destinar también cinco millónes a las unidades de apoyo con un incremento de casi un veinte por ciento y esto es un esfuerzo muy importante señora kortajarena las empresas de inserción también constituyen un modelo de éxito en euskadi y usted las conoce perfectamente

vamos a seguir impulsando las medidas puestas en marcha para primar el empleo en esos colectivos más vulnerables y a los incentivos para propiciar la contratación

y si en algún momento esas personas por su situación prelaboral no pudieran acceder a un mercado

y continuando con la dotación de ese fondo de veinte millónes de euros para su consolidación

es para mí un honor subir hoy por primera vez a esta tribuna lo es más aún para plantear una cuestión

se ha iniciado la fase de información pública correspondiente al proyecto de decreto por el que se regularán el régimen de concierto social y los convenios en el sistema vasco de servicios sociales

ha sido publicado ni es accesible así que a tenor de lo que pueda contener este decreto

qué va a hacer el gobierno vasco para garantizar unos servicios públicos de calidad que no abran la puerta a la mercantilización de los servicios sociales

pero sin embargo hay aspectos muy importantes que aún hoy en día todavía

nos preocupa la orientación que este pueda tener si frente a la indefinición actual

en la protección de unos servicios esenciales para nuestra sociedad o si va a suponer un paso atrás abriendo la puerta de par en par a empresas privadas con ánimo de lucro y a fondos de inversión y es que las empresas privadas los fondos de inversión los accionistas

lo cual es muy legítimo pero absolutamente incompatible con la prestación de unos servicios sociales con garantías y de calidad y esto no es que lo diga yo es que por desgracia tenemos numerosos ejemplos que respaldan esta afirmación tenemos por ejemplo

donde hace poco más de un año el servicio fue abandonado por la unión de empresas que la desarrollaba abandonado porque ya no le salía rentable si no podía seguir explotando a sus trabajadoras

cuando muchas de sus trabajadoras estuvieron casi un año huelga para denunciar no solo sus precarias condiciones laborales sino también enormes carencias en la prestación de servicio así claro era un negocio lucrativo que suponía un millón de euros al año en algunos centros lo que nos lleva a que un fondo de inversión pueda interesarse en la compra de residencia de mayores como acaba de hacer la sociedad de inversión inmobiliaria

una sociedad de inversión inmobiliaria ese es el modelo que queremos

legítimamente la cuestión es qué es lo que quiere poner en el centro este gobierno en materia de protección social

que lo está en materia de protección social es en gran medida porque cuenta con una nutrida base de entidades sociales

en su adn la vocación por ofrecer los mejores servicios posibles

en protección social es porque cuenta con una excelente red de profesionales y esta suerte este orgullo que tiene euskadi de contar con tal valiosos recursos ni llueve del cielo ni se riega sola

protección para nuestras y nuestros profesionales del tercer sector es por todas estas preocupaciones relativas al buen desarrollo de uno

y que se ve cada vez más amenazado por lo que preguntamos al gobierno vasco qué planes tiene

y cómo piensa proteger los servicios sociales de los riesgos que supondría su mercantilización y su apertura definitiva al interés por el lucro privado

presidente andrea señor ruiz en primer lugar agradecerle la pregunta que me realiza darle la bienvenida

a este foro a este pleno a este parlamento poder debatir con usted materias tan importantes como las que nos ocupan en este caso el decreto de concertación algo muy importante de cara a consolidar

que tenemos implantado en euskadi no me preguntaba que cuál era o cuál es el gobierno qué es lo que el gobierno quiere poner en el centro de las políticas

el gobierno pone a las personas en el centro de las políticas compartimos con

pero desde luego algo que hemos construido entre todos y todas a lo largo de muchos años

el gobierno lleva mucho tiempo trabajando con intensidad en este decreto para lograr el más amplio consenso posible sobre el decreto regulador con el concierto social y los convenios

así también como las entidades susceptibles de ser concertadas o convenidas los consensos no son fáciles de lograr y en esta materia

pero nos dan gran fortaleza y por eso lo que pretendemos es llegar a ese acuerdo a ese acuerdo

son muchas las reuniones y muchos los meses de trabajo está el decreto en un proceso ya muy avanzado y en aras al correcto desarrollo del mismo y al buen fin

se materialice ese decreto con todas las garantías posible estamos trabajando con discreción en nuestro compromiso de seguir garantizando unos servicios públicos de calidad

aquí para nosotros también el tercer sector es algo importante es una seña de identidad de este servicio de estos servicios sociales que tenemos en euskadi pero

desde la discreción para dar una respuesta personalizada integral eficiente y sostenible eskerrik asko artolazabal andrea

los servicios que estamos prestando tanto las administraciones locales como las forales nuestro objetivo proteger el modelo que tenemos un modelo que viene recogido en la ley y en esa ley sí que viene claramente y manifiestamente abordado que

para nosotros no es mercantilización la regulación del régimen de concierto como vía ordinaria para la participación en la iniciativa privada en la prestación de los servicios

posible recurrir a lo que es la concertación que tampoco es mercantilización la determinación por parte de la administración de los módulos económicos correspondientes a cada prestación y que no es mercantilización tampoco la toma en consideración de vínculos

vinculados al modelo comunitario o que vienen ya recogidos en el marco europeo ha habido una trayectoria inicialmente se empezaron con subvenciones posteriormente fueron convenios

trabajar desde el punto de vista de la licitación y la concertación y por tanto creemos que estamos en una nueva fase en esa nueva fase estamos trabajando de una forma muy intensa con el tercer sector y creo y espero que podamos conseguir consolidar el modelo que tenemos ahora

no de esos que proliferan en nuestros barrios pueblos y ciudades de mano de las casas de apuestas y los salones de juegos y que suponen también un riesgo real para nuestros y nuestras jóvenes

creo que en el proyecto de presupuestos cuando estuvimos presentando en la comisión de hacienda

mejoraba la situación de la ciudadanía vasca en concreto en el caso de los jóvenes y había uno que por ponerle un ejemplo decíamos que tendrían pondríamos en marcha

que han tenido alguna situación compleja que bueno no tienen esos apoyos y que entendemos que en este momento necesitan

tecnológicas digitales para poder hacerlo lo que sí también quisiera decirle es que durante esta legislatura

es verdad que durante esta legislatura

estimado oportunos y que por tanto los hemos revisado y en esa evaluación y posterior revisión hemos ido mejorando esas iniciativas que espero

dos mil veinte en esta cámara se va a debatir un proyecto de presupuestos que cuenta con doscientos setenta y cinco millónes en programas de empleo con un incremento de siete coma cuatro por ciento más y en eso estamos todos implicados además presentamos también un programa

de euros destinados a la formación y contratación de jóvenes en desempleo y además el año pasado pusimos en marcha y continuamos con unas iniciativas para las zonas de atención preferente con diez millónes de euros aparte de los que usted conoce perfectamente

yo sinceramente creo que tenemos

las hemos llevado adelante están teniendo resultados y la situación de los jóvenes en euskadi aunque es una situación complicada y dura sí que creo sinceramente está mejor de lo que estuvo

es verdad señora artolazabal ha superado el reto tenía escrito aquí no ha superado el reto lo traía escrito previamente pero me ha dicho una cuestión que es cierta que no estaba recogida en los presupuestos anteriores y es una cuestión

tiene muchísimas más competencias digitales que cualquiera de nosotros y nosotras y se lo puedo asegurar por lo tanto usted

no es ya que no tenga intención de dar un salto cualitativo no necesario para responder a la situación de la juventud en este país sino que es que no tiene intención

que era el motivo de esta pregunta por lo menos en cuanto a cuestiones centrales y nucleares respecta y no cambiar nada supone continuar como usted ha dicho

gaztelagun cuando estamos ante la tasa de emancipación más baja

eso sí usted ha anunciado a bombo y platillo que como gran medida que los y las jóvenes empadronados en euskadi recibirán la gazte txartela en casa dirá será en casa de sus padres porque no pueden acceder a una vivienda que le den las gracias por eso y no cambiar nada supone

y que lo único que hace es subvencionar el mileurismo y la precariedad y por eso solicitamos siempre con este tipo de cuestiones que el salario se establezca como criterio en mil doscientos euros el programa de retorno

se mantiene y de este casi mejor ni hablamos porque si atendemos a los resultados es como si no

y los y las jóvenes están hartando llevamos tiempo diciéndolo llevamos tiempo advirtiéndolo llenaron las calles contra el cambio climático salieron a la calle contra la sentencia del procés contra

y hoy mismo los y los jóvenes de este país van a tomar las calles de bilbo

de vida de las personas jóvenes siguen siendo muy muy precarias señora artolazabal dar un salto nuevas medidas es lo que quieren quieren tener buenas expectativas en sus proyectos de vida lo que quieren al fin y al cabo es tener vidas dignas de ser vividas y por eso y para reivindicar eso saldrán
hoy a las calles de bilbo y para decir alto y claro que esto no es lo que hay eskerrik asko estarrona jauna artolazabal andrea zurea da hitza

señor estarrona por su inquietud no y además que como le digo la compartimos pero también la realidad es

en el año dos mil dieciocho diez mil doscientos cincuenta y nueve personas jóvenes tuvieron acceso a una oportunidad laboral

han sido en el año dos mil diecisiete han sido seis mil ochocientos cincuenta y seis perdonen

es verdad que tienen una situación complicada la misma que tuvimos los demás cuando fuimos jóvenes a falta de cerrar este

el paro ha disminuido en el ámbito de la juventud y además ha disminuido de una forma muy importante la cifra de jóvenes menores de treinta años en euskadi en situación de desempleo ha bajado desde el dos mil ocho de treinta y seis mil doscientos diez a

un veintiocho por ciento menos es verdad que tenemos que seguir trabajando pero también es verdad que

creo que con las herramientas y las actualizaciones de los programas que estamos poniendo en marcha vamos a ser capaces de mejorar esas situaciones desde el departamento de vivienda se está trabajando en el ámbito de la vivienda con el programa gaztelagun se está reformando se está mejorando

no puede mejorar por tanto nosotros estamos dando oportunidades estamos mejorando y estamos evaluando aquellas que no funcionan eskerrik asko artolazabal andrea

gracias señora presidenta consejeros consejero buenos días señor consejero el proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio dos mil veinte en su disposición

modifica la ley uno barra dos mil seis de veintitrés de junio de aguas en relación con el canon

mediante esta propuesta se produce una modificación del tributo del canon del agua afectando a la delimitación del hecho imponible el canon la base imponible

antes era el consumo ahora es la captación el tipo impositivo momento del devengo así como la creación de supuestos de no sujeción antes contemplábamos como exenciones y la reforma del régimen de exenciones y bonificaciones

ahora se pretende que el hecho imponible sea la captación de aguas continentales para su utilización o consumo y se devenga en el momento de la captación actualmente con la norma vigente el hecho imponible lo constituye el consumo real

del consumo de tal manera que con la ley vigente se estimula el ahorro de agua si haces un buen uso

abierto lógicamente en la propuesta de modificación el hecho imponible es la captación

que deja de ser el consumo el hecho imponible es la captación y la pagaremos como tal como captación consumamos o no y además pagaremos las pérdidas y fugas de las tuberías de tal manera

más canon recauda el gobierno a costa del consumidor claro consuma o no el gobierno señor consejero le preguntamos por este asunto en la presentación del presupuesto y fue sorprendente la respuesta máxime cuando

nos decía que es una iniciativa que viene fundamentalmente por parte del departamento de hacienda pero que usted la comparte plenamente y señor consejero

y tributario en materia de aguas y obras hidráulicas por lo tanto usted señor consejero es quien establece el régimen tributario en materia de aguas no se meta bajo el ala del consejero de hacienda

qué pasa con los gestores señor consejero porque

recaudará más de tal manera que desmotivan a los consorcios a los ayuntamientos a las mancomunidades a las entidades gestoras para que mantengan en condiciones

los costes los pagaremos entre todos a escote los consumidores

de tal manera que esta modificación va a pasar de recaudar dos millónes de euros a recaudar siete millónes de euros decía usted cantidad

no es ninguna tontería a pagar por los consumidores y no con criterios medioambientales sino a iniciativa de hacienda puro recaudatorio en vez de primar el consumo responsable fomentan el despilfarro

competencia como le decía antes de ayuntamientos de consorcios cuanto más despilfarro de agua por falta de inversión pública pues mayor recaudación verdad señor consejero

en qué punto es exigente para los consorcios de las modificaciones que ha propuesto por artículos en qué punto es exigente para los ayuntamientos para los consorcios para las comunidades metros captados metros que repercuten a los consumidores

obligatoriedad de mantener la red en condiciones óptimas en ningún sitio en qué parte de la modificación está esa exigencia que usted dice

para el grupo popular aquí hay un interés meramente recaudatorio por encima de cualquier interés medioambiental y repercutido directamente a los consumidores canon que irá subiendo a interés del gobierno

treinta cincuenta lo que quieran subir lo que estimen oportuno por necesidades como es para hacer obras y

de los ayuntamientos de las mancomunidades de los consorcios pues lo que haga falta verdad es que hay que pagar las obras con el coste de lakua pero la consumamos

de esta modificación usted cree que esta modificación cumple con los objetivos de la ley eskerrik asko

señora lópez de ocariz le respondo a su interpelación el propósito del gobierno para modificar

referidos al canon están claramente recogidos en la memoria explicativa que sin duda usted conoce esta modificación es consecuencia de una reflexión conjunta realizada por la dirección de administración tributaria es decir el departamento de hacienda y de la agencia

sobre cómo mejorar el cumplimiento y la eficacia del canon del agua cuando se ha cumplido ya diez años desde su entrada en vigor el uno de enero de dos mil nueve

por una parte avanzar en el cumplimiento del principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua como sabe

en la protección de los recursos hídricos es la directiva marco del agua de la unión europea que define los objetivos

e impone las condiciones para la utilización sostenible uno de sus pilares es el principio de recuperación de los costes de los servicios establecidos en el artículo noveno en otras palabras la obligación

de incorporar en las tarifas de suministro el valor real de lo que cuesta todo el ciclo del agua desde que se capta hasta que se devuelve a los cauces

incluidos los costes medioambientales y ello

y responsable de este recurso natural así con la modificación planteada se acerca

al impacto producido sobre el medio ambiente en segundo lugar simplificar los trámites administrativos a la hora de aplicar y recaudar el canon

y además fomentar la reutilización del agua un aspecto que hasta ahora no estaba suficientemente ponderado y que es fundamental para reducir el consumo

y la ganadería lo cierto es que con la regulación actual del canon no todos los usos del agua contribuyen a recuperar los costes de los daños

no están gravados la ley de aguas sí incluyó en el canon

pero el decreto que la desarrolló introdujo la excepción provisional

realizados para usos domésticos la ley también aplicaba el canon a los consumos de usos

a raíz de la petición parlamentaria realizada el dieciocho de noviembre de dos mil nueve se estableció una moratoria en la aplicación del tributo a estos cursos

de este modo actualmente no están sujetos al canon los usos domésticos

o las pérdidas y fugas incontroladas de las redes de captación y suministro porque el hecho imponible es el consumo real o potencial simplificando el volumen de agua

del grifo esto lleva a que solo un treinta coma cinco por ciento del consumo real en euskadi sea objeto de imposición por el canon del agua que afecta

y municipal con un tres coma ocho por ciento por otra parte

del treinta coma cinco por ciento al catorce coma seis por ciento el porcentaje de consumo gravado efectivamente por el canon del agua

con la modificación de normativa propuesta que incluye una nueva definición del hecho imponible

se pretende avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la ley uno barra dos mil seis que establece

de esta forma se progresará en el cumplimiento del principio de recuperación de costes medioambientales los cambios propuestos en el capítulo referido al canon no suponen una modificación sustancial de una ley que es mucho más amplia la finalidad del gravamen

un uso más responsable eficiente y sostenible del agua de modo que su recaudación debe destinarla ura según establece la propia ley a la protección restauración y mejora del medio acuático y a colaborar con las administraciones competentes

y saneamiento fijar que el hecho imponible será la captación del agua para su uso y no el consumo real como sucede hasta ahora

y lo mismo sucede con la exclusión del canon para el agua que sea reutilizada en usos industriales de otro tipo y con la fijación del tipo de gravamen u otros detalles se trata de modificaciones de carácter técnico

canon además se han propuesto

de los diferentes agentes implicados concretamente los consorcios gipuzkoako urak

a una amplia mayoría de los usuarios de la red de agua de euskadi unos consorcios que a su vez venían reclamando una gestión del canon más sencilla

que podría haberse abordado estos cambios mediante una modificación de la ley de aguas sí se podía haber hecho pero usted y yo sabemos lo que eso supone en tiempo para abordar los retoques que insisto

creemos que el proyecto de ley de presupuestos es una vía perfectamente adecuada para tramitarlos y que garantiza el grado suficiente de información de contraste y debate político sobre su

por otro lado hay que situar la cuestión del canon en sus justas dimensiones gravando como decía únicamente el catorce coma ocho por ciento del consumo real de agua se ingresan con él dos millónes de euros con los cambios propuestos el canon gravaría el cien por ciento del volumen de agua captada para su utilización o

aunque el porcentaje efectivo se reduce al ochenta y cinco coma tres por ciento debido a que el volumen que utilizan en las explotaciones agrarias y ganaderas tendrían una bonificación del noventa por ciento en otras palabras el sector primario únicamente va a pagar el canon por el diez por ciento

como ve señora lópez de ocariz se ha sido sensible con un sector que tanto

tenemos siempre muy presente por otra parte y pensando en el conjunto de los sujetos pasivos del canon

a un volumen de agua que multiplicaría por seis la cantidad actualmente gravada y así se plantea la reducción del tipo actual a la mitad tres céntimos por metro cúbico de modo que la recaudación estimada

de euros anuales respecto a la cantidad actual supone un incremento llamativo es verdad

para el fin pretendido que es compensar el deterioro ambiental que causamos

y propiciar un consumo eficiente y responsable además con el fin de facilitar las adaptaciones necesarias en la gestión por parte de los entes suministradores se plantea que los cambios indicados entren en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno se da por lo tanto un amplio margen

señor consejero una modificación de estas características

ayer mismo debatíamos una proposición de ley que trajo su grupo junto con los nacionalistas vascos para modificar dos artículos de la ley tres

similares una proposición de ley no por la puerta de atrás señor consejero

esta modificación ninguno mire yo creo que es importante porque ayer también veíamos una respuesta del gobierno a una proposición de ley de bildu que decían no aceptada

aportaba informes oiga ustedes tienen criterios dependiendo de qué

recaudatorio que está claramente manifiesto y creo que usted lo dijo muy bien que está plenamente de acuerdo y que es hacienda quien dirige esto y no hay más no hay un informe socioeconómico no hay un informe medioambiental del cumplimiento de la directiva del agua no hay un informe del consejo del agua del país vasco que lo debe de haber no hay un informe de la agencia vasca del agua que lo debe de haber no tiene informe vinculante de la asamblea de usuarios dice que ha hablado con tres consorcios

tres consorcios que están arruinados no tiene informe vinculante de la asamblea de usuarios sobre la modificación del canon tal y como le corresponde según el artículo

entre otros dice tratamiento y planificación integral económica del agua sostenibilidad del recurso y utilización racional del agua a ustedes

lo vamos a pagar entre todos a escote no les importa absolutamente nada otro de los principios generales coordinación

señor consejero transparencia esto no lo han llevado a la asamblea de usuarios transparencia participación de las personas y entidades usuarias elaboración y aplicación de la política del agua pues no dice que ha hablado con tres consorcios claro prestación eficaz de los servicios públicos

teniendo como objetivo el abastecimiento universal no la recaudación universal como proponen ustedes

responsabilidad y pago de los costes producidos en la gestión y uso del agua por quien la usa no por quien la despilfarra

el despilfarro de los gestores y eso aquí sí se va a producir con esta modificación sí se produce porque pagamos en la captación lo que pase después a ustedes les importa muy poco

ese informe quiero el informe que me diga que medioambientalmente eso es así qué menos que aportar un informe porque aquí

a mí que un socialista me pida fe me sorprende qué quiere que le diga me sorprende y mucho no señor consejero esto tiene que venir

con quiénes han hablado ustedes con las juntas administrativas con los ayuntamientos no con quién con tres consorcios hombre señor consejero

a siete y eso año a año nos va a llevar a tener cincuenta millónes de ingresos en muy poco tiempo y aquí pagando a escote el consumidor

no hombre te voy a devolver un poquito ya voy a hacer yo un plan de ayudas para aquellas economías más débiles para que no paguen

deducirles unos costes no entonces me roban la cartera entera y luego se quedan con el ochenta por ciento y el resto lo reparten como ustedes

su social la parte social del partido socialista esa es con el dinero de los demás hacen la obra social mire la captación sí es una modificación del todo cambiar el hecho imponible es una modificación sustancial del canon es que es la parte importante esta ley tenía dos partes la creación de la agencia del agua y el canon y me dice que no es una modificación sustancial pues nosotros entendemos que sí

me habla del sector agropecuario eskerrik asko lópez de ocariz andrea señor consejero

podemos hablar largo y tendido sobre esta cuestión pero creo que le he expuesto de forma argumentada y consistente las razones por las que hemos decidido abordar las modificaciones planteadas con la aplicación del canon del agua

no tienen carácter sustancial estamos hablando de la ley de aguas que es mucho más que el canon y además va en línea con el espíritu de la propia ley de aguas

y quizá más idónea a día de hoy que iniciar

en estos momentos porque por esa vía seguro que los cambios técnicos propuestos no se podrían abordar en lo que queda de legislatura y muy probablemente tampoco en el primer año de la próxima legislatura considero por todo ello que quizás estamos desenfocando el sentido de la finalidad

dos años a día de hoy sino restaurativa y ambiental

el canon va algo más allá y pone el acento en los costes ambientales que conllevan

la utilización eficiente y sostenible dice usted que les importa las fugas

si no se paga si no están sujetas al canon da igual las fugas que haya ahora sí van a pagar y ahora por lo tanto tendrá que haber

porque van a pagar canon de agua antes cuando no se paga aiba

no hay ningún interés en reparar en las fugas por qué entre otras cosas porque no se paga el canon ahora se va a pagar

el uso racional y el consumo porque es precisamente al revés su interpretación

para cambiar el hecho imponible pasando de lo que era el consumo real del agua que sale del grifo o de las tuberías

al volumen de agua captada en origen porque es esa cantidad de llegue o no llegue a consumirse finalmente

de la detracción de este recurso natural y de su devolución al medio una vez utilizado

también suprimir las exenciones que existen en la aplicación del canon sobre determinados usos con la excepción del agua reutilizada

modificándose ya le he dicho antes la captación para usos agrícolas y ganaderos con el fin de no perjudicar la viabilidad de las explotaciones

el impacto económico es bastante moderado estamos hablando de una recaudación prevista de siete millónes de euros aunque implique triplicar la actual recaudación que es ridícula

y le insisto esto no es un debate tributario ni económico aunque los cambios en el canon

es un debate ambiental y obligado además de una forma por la normativa europea en la que se basa la ley de aguas y estando como estamos por lo menos en teoría

por la acción humana y por la amenaza que supone el cambio climático para recursos naturales que resultan vitales

que contribuyen a su preservación y esta en su modestia es una de ellas en su modestia señora lópez de ocariz estamos hablando

millónes en todo euskadi a siete millónes ampliando la

y con las modificaciones que se introducen aquí estamos hablando de que el canon supone tres céntimos de euro

captados tres céntimos cinco pesetas de las antiguas nosotros somos de la quinta estamos hablando de estimativamente en cinco millónes la recaudación estamos hablando de que si los repartiéramos estos cinco millónes por los habitantes que somos en

supondría dos coma cuarenta euros por habitante por persona y año es decir cero coma veinte céntimos por habitante al mes

terrible inasumible por parte de lo que son los contribuyentes las familias que en última instancia lógicamente

el canon del agua estas cantidades absolutamente inasumibles que le estoy diciendo a usted

aquí lo que hay en estos momentos es que por parte del gobierno de españa se plantea una serie de discrepancias a la ley aprobada por el parlamento se pone en conocimiento del gobierno vasco

y se abre esa vía negociadora eso es lo que hay a día de hoy y lo que tengo que decirle es que lógicamente desde el gobierno utilizaremos todos los resortes que estén en nuestra mano

se atiende estrictamente a las competencias que tiene la comunidad autónoma y lograr así que no se llegue a recurrir por parte

me alegra escuchar esa respuesta porque a veces aquí se traen preguntas para escuchar lo que uno no quiero oír y criticar haber oído lo que uno no quería haber oído

para evitar esta injerencia esta intromisión este ataque a mi modo de ver a la autonomía política de este parlamento y también a la decisión mayoritaria de la sociedad vasca porque esta es una ley que cuenta con un amplísimo consenso esta era una ley que estaba jurídicamente blindada es una ley y es verdad y incluso desde esta tribuna en algún momento a

se agilizaran determinados plazos se hizo rápido en su fase de tramitación parlamentaria pero tiene detrás un ingente trabajo político social y jurídico y esta ley era una ley que estaba absolutamente blindada pero absolutamente blindada

tenía un punto débil estaba blindada contra lo que estaba blindada estaba blindada basándose

expertos en la materia contra un ataque en nombre de la defensa de la competencia en nombre de la directiva europea de servicios

elementos jurídicos que han servido en otros momentos para atacar este tipo de leyes

para lo que no estaba blindada era para un ataque por la espalda como el talón de aquiles

por tanto le pido no solo que haga todos los esfuerzos posibles para convencer al gobierno central de la constitucionalidad de esta ley que por cierto

o sea si no podemos ni regular los centros comerciales como entremos a temas que tengan que ver con la identidad con la soberanía con las relaciones internacionales

regular desde madrid en el marco de nuestras competencias con una ley perfectamente blindada con una ley que tiene un consenso absoluto de este parlamento y sobre eso también tienen que ponernos pegas yo le pido y le exijo que cumpla lo que ha dicho que consiga que se retire esa ley porque si no nos veremos

señor casanova vamos a poner las cosas en su sitio claro que no es agradable que te recurran una ley y más

pero sucede sucede tanto por parte de la administración del estado

ni que uno cuestione el autogobierno tal y el otro cuestione la soberanía nacional

esté en su mano esto forma parte del juego democrático señor casanova

forma parte de juego democrático ya sé que usted es nuevo en esto igual no pero forma parte de esto

un anuncio de recurso no llega finalmente al tribunal constitucional debido a que una de las partes convence a la otra de que no están justificados los reparos puestos en la misma

pues hasta marzo más o menos desde el gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios

en la comisión bilateral y para que el recurso anunciado no llegue a plantearse

ya sabemos que se ha tomado usted esta ley muy a pecho y que puedo entender

ante la posibilidad de que pueda ser recurrida pero también

porqué insistimos tanto desde nuestro departamento en que la norma que sustituyera al anulado plan territorial de equipamientos comerciales debía hacerse con plena de garantías jurídicas

es decir que las limitaciones a la creación o ampliación de grandes centros comerciales fuera de las áreas urbanas no podía justificarse por motivos económicos o comerciales algo

sino en razón a las afecciones que causan en el medio ambiente la ordenación del territorio la movilidad y el paisaje

de la comunidad autónoma quiero recordarle que la primera intención de su grupo pero también de elkarrekin podemos y del partido popular fue abordar esta materia modificando la ley de actividad comercial lo que habría supuesto incurrir en el mismo error

es decir declarar expresamente que el motivo de la regulación era proteger al pequeño comercio local frente a las grandes superficies y abocar la ley entonces sí o sí a un recurso con resultado adverso asegurado afortunadamente

se terminaron aceptando nuestras consideraciones y fue posible aprobar por unanimidad la ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales

y que se lo reitero vamos a defender con todo rigor y convicción en las negociaciones con el gobierno central para evitar que sea recurrida y si no convencemos también la defenderemos

legebiltzarkideok martínez jauna agradezco su interés y su pregunta

que la reorganización de servicios en el centro de salud de la merced se encuentra enmarcada en la creación de un área de salud única junto con el centro de miribilla en ningún caso va a suponer una pérdida o menoscabo en la calidad de atención

contar con el centro de miribilla permite redimensionar los recursos disponibles en unas instalaciones amplias para los profesionales y también para la población de la zona así la osi bilbao basurto

de miribilla y la merced constituyendo como ya he mencionado en alguna ocasión una única unidad con el centro de salud de miribilla este sería el centro de cabecera en horario de ocho a ocho y el centro de salud

el de la merced periférico en horario de ocho a tres pero esto no se trata de ningún experimento este mismo modelo estructura

realizándose en otras zonas como puede ser la unidad que constituyen basurto con altamira o la unidad de deusto con arangoiti

que este modelo asegura unas mejores condiciones tanto de espacios como de organización de servicios asistenciales dando una atención de ocho a ocho más accesible y próxima en el conjunto de lo que precisa un área de salud

señora murga nos preocupa la situación de la atención primaria como usted bien sabe no solo por este

nuestras la atención primaria es una columna vertebral del sistema de salud pero es una columna vertebral que debería ser enraizada con la comunidad sanitaria con las trabajadoras y trabajadores y también con los vecinos y con las vecinas sabe usted mejor que yo los problemas de personal que se arrastran en atención primaria y ahora mismo tenemos

y recortes también de servicios en el centro de la merced que es el que nos ocupa y en el pac de

que ve mermado su derecho a una salud pública de cercanía de calidad e integral

allí para el personal del centro y allí se les anunció esa unificación por decreto con miribilla se daban razones de espacio de organización planificación de miribilla para el cambio

sabe además o lo debería saber que no hay transporte público entre los dos barrios entre san francisco y miribilla y que la distancia no es muy grande pero que las cuestas son más que pronunciadas y parece un problema muy serio para la cantidad de personas mayores que viven en el barrio

para las personas que necesitan ir al centro salud con carritos de niños

unificaciones que se va a hacer el servicio materno infantil en miribilla luego los plazos para el traslado primero fue mes y medio luego fue diciembre luego fue que después de navidad porque

un tanto improvisada nosotros nos preguntamos si son necesarios esos cambios porque no lo sabemos

del centro de salud no ha participado en esa decisión tampoco ha participado de esa decisión ni ha sido informado

el barrio de san francisco los ciudadanos y las ciudadanas que usan este servicio ni la comisión sociosanitaria ni el consejo clínico asistencial tampoco

y toda la información que tenemos nos hace pensar que improvisada de la osi bilbao basurto desde elkarrekin podemos defendemos la sanidad comunitaria

plurales pero también un barrio con fuertes tasas de exclusión social que son urgentes de solucionar si nos creemos eso de que no se tiene que quedar nadie atrás

de dos años inferior que la del barrio de deusto o cinco años que respecto al barrio de indautxu y la sanidad la salud el derecho a la salud es

zentroko zerbitzuak murriztea da reconsideren esta decisión señora murga están a tiempo

lo hagan en coordinación en comunicación en diálogo en debate con los trabajadores y las trabajadoras de los centros de salud y con los vecinos y vecinas

también nos preocupan las desigualdades que existen y conocemos y también ponemos medidas desde el punto de vista de salud comunitaria para estas desigualdades pero lo que quiero dejar claro es que en ningún momento estos cambios van a reducir la atención de las personas que viven en estos barrios no tenga ninguna duda repito no va a afectar a su atención es una reorganización porque el centro de salud de la merced no tiene posibilidad de ampliación y hasta ahora

de miribilla a realizar una atención en ocasiones con la matrona para unas actividades y otras para una diferente y se va a unificar por este motivo

el centro de salud de miribilla es un centro de reciente creación dos mil quince que dispone de unas instalaciones amplias que pueden acoger sin ningún problema un incremento de la población que está prevista para estas áreas y también la reorganización de profesionales como ejemplo tiene unas instalaciones para la atención después del parto a las que ya acudían previamente

así como existía la necesidad de compartir consulta por parte de profesionales dando una gran esto lo tenían que hacer en la merced

este ha sido el motivo por este motivo se ha constituido una unidad maternoinfantil única en el centro de salud de miribilla para atender a ambas poblaciones

la población pediátrica de la merced ya venía siendo atendida en horario de tres a ocho de la tarde en el centro de miribilla por esta imposibilidad que siempre ha habido de que toda la población pudiera ser atendida

hace exactamente un mes el pasado veintinueve de octubre nos anunciaba en este parlamento en comisión que el boletín oficial del país vasco publicaría

la suspensión cautelar de las once oposiciones médicas de dos mil dieciocho investigadas por la juez de vitoria la señora ana zulueta después de que la fiscalía hallara indicios de irregularidades y filtraciones

y que las personas implicadas y afectadas con esta medida se enterarían vía boletín sin embargo ambas partes se enteraron antes por la prensa algo que se ha ido reiterando este año y medio y que refleja la gestión de su departamento o que su departamento ha desarrollado en las denominadas ope dopadas

por ello presentamos una iniciativa conjunta junto con eh bildu en la comisión de salud para suspender cautelarmente

clarificasen y dictasen resolución judicial dicha proposición no de ley

y no salió adelante por no contar con los apoyos suficientes y con críticas de los grupos que sustentan a su gobierno y que manifestaron entonces que era una medida inadecuada

sobre todos los procedimientos de la ope exceptuando los tres de los que ya se había decidido repetir los exámenes en su totalidad o parcialmente

que la medida seguirá vigente hasta que los tribunales adopten una decisión en uno u otro sentido en tres de estas categorías anestesia angiología y digestivo están imputados los autores y autoras de los exámenes teóricos las otras ocho

cirugía plástica urología medicina intensiva urgencias microbiología y cirugía cardiovascular el director general de osakidetza remarcó que se había adoptado esta decisión por la preeminencia de la jurisdicción penal

que no se puede hacer no se pudo hacer en febrero porque no había diligencias judiciales y no sabían el número de categorías que se estaban investigando y en mayo y en junio julio agosto septiembre en realidad ya nos tienen acostumbradas a llegar tarde

elevan hasta diecinueve las especialidades bajo sospecha

no veía motivos para adoptar medidas y se procedió a la asignación de las plazas con toda normalidad

una de la solicitud de ampliación e investigación de dicho juzgado viene desarrollando en torno a la denuncia del fraude de la ope

por ello solicitaron ante el juzgado que la investigación se ampliase en dos nuevas especialidades una ya señalada como sospechosa por la fiscalía neurocirugía y otra con nuevos indicios neurofisiología adjuntando las pruebas necesarias

como señaló ya neurocirugía era una de las categorías señaladas por la fiscalía

como se quiso correr tanto para cerrar el proceso lo antes posible tal y como mencionó el señor orbegozo ahora se encuentran con una especialidad investigada

legebiltzarkideok señora macazaga como ya anunciamos en esta cámara

once procesos selectivos respecto a los cuales el auto del juzgado número dos ha abierto diligencias previas

es cautelar de manera que es posible levantarlas si las decisiones de la jurisdicción penal así lo justificaran como pudiera ser el caso de que finalmente hubiera sobreseimiento o archivo de las actuaciones

esta suspensión cautelar se ha llevado a cabo para garantizar los derechos de los y las opositoras y para que ninguna actuación administrativa

con el fin de preservar la seguridad jurídica a partir de ahí esto es lo que

ningún otro auto o requerimiento por parte del juzgado ni respecto a ninguna otra categoría

a cualquier ampliación de petición de información o de documentación y por lo tanto nuestra responsabilidad es por una parte colaborar con la justicia y por la otra velar por los y las opositores que se han presentado tomando las medidas necesarias con rigor e intentando salvaguardar

le recuerdo que el auto del seis de marzo del juzgado número dos acordó abrir estas diligencias y las once categorías incluidas por la fiscalía y este

son los once procesos selectivos suspendidos cautelarmente y recuerdo a esta cámara que las y los opositores de las categorías

a que se resuelvan sus procesos en definitiva entre las categorías incluidas por el auto del juzgado no está contemplada en la categoría de neurocirugía en consecuencia

no la suspende cautelarmente durante todos estos meses hemos dado sobrada de nuestra voluntad de responder a lo que nos solicita el juzgado y de tener responsabilidad jurídica con cautela y colaborando

también con el ararteko con este parlamento y por supuesto como he mencionado con la justicia mientras tanto seguiremos trabajando por resolver las categorías pendientes de la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete que no están

porque es entre otras cosas necesario para poder preparar y poner en marcha el siguiente proceso selectivo que es la ope

esta es la forma que tenemos de dotar de estabilidad y empleo de calidad a los

eskerrik asko presidente andrea sailburua sailburuak egun on bueno también preguntamos por otro centro de salud

señora consejera como usted bien sabe el local que albergaba el centro de salud de zambrana presenta problemas estructurales que parece que se fueron agudizando

del primer semestre del año pasado y finalmente se procede a trasladar la atención que se prestaba en el local habilitado para el centro de salud de zambrana a otro

se trasladan a otro local del propio municipio de zambrana como usted también sabe el propio ayuntamiento

de titularidad municipal para la construcción de un nuevo centro de salud y lo que queremos saber es señora consejera puesto que la competencia

si es criterio del gobierno vasco y del departamento que usted dirige y de osakidetza dar solución a la atención sanitaria en esta importante zona de álava

a ofrecer a todos los vascos y vascas atención sanitaria de calidad y para ello trabajamos en mejorar la atención primaria en todos los municipios de euskadi

como ambas sabemos y ha mencionado este verano por circunstancias ajenas

relacionadas con problemas estructurales del edificio hubo que cerrar este consultorio en zambrana que ya afectaba a la seguridad

así durante este cierre se atendió a los vecinos y vecinas

el nueve de septiembre el ayuntamiento de zambrana habilitó una alternativa en la biblioteca del municipio para evitar estos traslados mientras para reparar la estructura del edificio donde se encontraba el consultorio

a la diputación foral de álava ayuda que la diputación ha concedido por su parte el ayuntamiento de zambrana

para la construcción de un nuevo consultorio pero valoradas las dos alternativas

en el que se encuentra el consultorio y aprovechar las obras para adecuar los espacios y mejorarlos eskerrik asko eskerrik asko murga andrea

yo creo que nos lo sabemos muy bien usted y yo por cierto junta administrativa no junta de administración eso es otra cosa

sí pero como usted sabe lo que es sanidad y la prestación de la asistencia sanitaria primaria es una competencia del gobierno vasco efectivamente

de la diputación a través del plan foral de obras y servicios parece ser que esa es la intención pero la pregunta es muy concreta señora consejera usted tiene intención

para solucionar el problema de la atención sanitaria en esta

sí o no esa es la pregunta usted ya tiene a disposición un local cedido por el ayuntamiento usted está dispuesta como han hecho en otras zonas de álava por cierto no sé si porque son gobernadas por alcaldes del partido nacionalista en donde se han construido centros de salud a dar

y construir un nuevo centro de salud usted sabe muy bien que los problemas de dicho local no son problemas puntuales es decir no son problemas

con aspectos coyunturales sino más bien con aspectos también importantes que tienen que ver con la accesibilidad al propio edificio que se accede a través de una rampa con que los espacios

estrechos en los que los pacientes tienen dificultad para moverse cuando acuden al centro de salud también espacios inadecuados

ubique el personal médico baños no adaptados a personas

usted personalmente y como responsable del departamento de salud cree que todos estos problemas que presenta este local se van a solucionar

envergadura y por lo tanto que requiere de una solución de mayor envergadura

consejera viendo que difícilmente se van a solucionar todos los problemas del local al que estamos haciendo referencia es intención desde el gobierno vasco y del departamento que usted preside como ha hecho en otras zonas

construir un centro de salud viendo que además el ayuntamiento ha mostrado su disposición cediendo un local de forma gratuita sí

le he respondido que la decisión era actuar sobre el edificio existente y no construir uno nuevo esa ha sido aparte del histórico

su corrección sobre la junta administrativa de zambrana que es partidaria de rehabilitar el edificio en el que actualmente se encuentra este consultorio

además el alcalde de la localidad se ha mostrado conforme con esta decisión y le puedo asegurar que el plan de inversiones se hace público lo conocerán ustedes y si en algún momento se decide la construcción de un edificio nuevo se incluirá

y se hará pero en este momento la partida que tenemos

para una habilitación de un edificio en el que se van a modificar accesos como la accesibilidad y todos aquellos y tenemos unos estándares

que cumplimos y que en las reparaciones estructurales de los edificios también mantenemos

en breve se van a iniciar las obras de remodelación en el consultorio de zambrana con la ayuda de la diputación foral de álava y también señalarle que aspectos como accesibilidad se van a poner totalmente

a los meses del año anterior del dos mil dieciocho con un aumento en porcentajes muy similares

mirados los datos de julio agosto y septiembre pues podemos ver que esta tendencia sigue igual aumentos de turistas en gipuzkoa siete coma seis en bizkaia siete coma dos y en álava un descenso del tres por ciento

la tendencia es muy similar gipuzkoa un aumento del cuatro coma cuatro

si vamos al mes de octubre por ejemplo el último dato que tenemos la entrada de turistas

esta tendencia señora consejera nos preocupa y seguro que a usted también como le decía los últimos meses de este año los datos de turismo en álava

parece que se cronifica si miramos el conjunto del país vasco los datos no son

pero por contra álava cae sistemáticamente y señora consejera qué valoración hace de estos datos de descenso continuado en los últimos meses del turismo en álava

si han valorado qué factores pueden estar incidiendo en estos datos

de los tres territorios cómo puede influir esto en que sea la única capital donde los porcentajes de turismo llevan bajando durante más de seis meses

gracias presidenta sí señora

efectivamente usted mencionaba unos datos concretos me va a permitir que le presente también el resultado que hemos realizado desde el órgano estadístico del departamento antes de todo sí quería transmitir que los datos no marcan aún una tendencia asentada ya que se han dado fluctuaciones en el pasado y también recuperaciones de flujos y pernoctaciones

por lo tanto hemos analizado el periodo comprendido entre mayo y octubre

los agroturismos se mantienen incluso aumentan un diecinueve por ciento más de viajeros superior a la media de euskadi

y en menor medida en vitoria que básicamente se da a partir de abril del dos mil diecinueve el resto de álava crece

significativo pero ha subido por mercados también hay que destacar que la representación del turismo residente en álava es mucho mayor que en bizkaia y en gipuzkoa

entonces las variaciones en el mercado español obviamente le afectan mucho más y los mercados emisores los principales que son madrid cataluña y andalucía es verdad que
comparativamente han disminuido su número de viajes totales isiltasuna mesedez

y francia que es uno de nuestros principales mercados extranjeros ha disminuido un cuatro por ciento en euskadi y eso ha hecho también un efecto arrastre en el territorio no obstante si atendemos al porcentaje de ocupación y a la estancia media

lo que para nosotros también es un dato positivo ya que aun estando registrando un menor número de viajeros desde mayo es cierto que

para nosotros el objetivo de crecimiento no es un objetivo en sí mismo sino seguir creciendo también en calidad

del territorio y también por supuesto seguir incrementando la estancia media gracias

hay que valorar no nos dice cuáles son si han evaluado cuáles son los elementos que hacen que esa pérdida de turismo y yo creo que eso tienen que evaluar tienen ustedes los datos y me gustaría que nos lo diga porque

y señora consejera quiero decirle que estamos preocupados por esta tendencia preocupados porque esta tendencia

relevantes en el entorno competitivo y el sentir ciudadano sobre el turismo

y además en vitoria coincide otro elemento básico que es el decaimiento del comercio es tremendo el cierre de comercios usted tiene los datos también por lo tanto creo que unido al descenso de turistas más la situación del comercio

languidece en estos cuatro años de una manera bárbara es tremenda la situación y por lo tanto señora consejera creo que tienen que hacer un análisis específico de lo que está pasando

y creo que todas las administraciones deberían de estar preocupadas nosotros estamos preocupadas y yo creo que lo que decía esta situación nos obliga a estar muy atentos y requiere de una

respetando el entorno el bienestar la calidad del empleo mejorando e incorporando la digitalización a todos los eslabones de la cadena turística en definitiva generar competitividad turística diferenciada

vitoria y álava necesitan un plan específico para revitalizar el comercio y para realzar aquellos factores turísticos que tenemos y muchos y están tapados creo que todas las administraciones diputación ayuntamientos

sí gracias presidenta sí señora lópez de ocariz efectivamente todavía no podemos hablar como le decía antes de una tendencia asentada

el origen de los datos de las causas de los mismos efectivamente y también de las percepciones del sector como decía es verdad que estamos registrando una

está incrementando la estancia media y el grado ocupación con lo cual tenemos que analizar bien qué es lo que está pasando porque a día de hoy es cierto que aun entrando algo menos de turistas fundamentalmente en hoteles rioja alavesa y también por el arrastre de la

se está produciendo esa disminución pero también se están quedando más tiempo esos viajeros nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando y promocionando

con el foro de ecoturismo y con todas aquellas acciones como por ejemplo la que hemos presentado

con todos los patrocinios que tenemos seguir impulsando efectivamente el festval los festivales de jazz los congresos miniature

etcétera y bueno recientemente ahora mismo inmediatamente también salinas de añana es un recurso donde precisamente celebramos el encuentro

y la adhesión a la red precisamente de recursos industriales o sea que no nos va a faltar la atención y la promoción de todos estos recursos y como digo seguiremos analizando los datos

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno buenos días a todos les tranquilizo porque yo subo hoy a la tribuna no a insultar a nadie ni a faltar al respeto

porque creo que ese no es el juego parlamentario yo lo que quiero hoy es interpelar a la señora beltran de heredia nuestra consejera de seguridad sobre la eficacia y la eficiencia

de la policía vasca y me alegro que esté presente también la señora san josé porque algunos de los comentarios o sugerencias que quiero hacerle pues le pueden afectar también a su departamento

que se mezclan muchas veces pero que no son lo mismo señora beltran de heredia

para ver cómo evoluciona la labor policial y la gestión que sobre esa policía hace usted y su equipo

no concretamente es decir no vamos a hablar de datos no nos vamos a meter en una ensalada de números que siempre son interpretables los últimos datos que nos ha facilitado usted

los hechos delictivos conocidos por la policía sé que hay muchas causas pero por eso le digo que no quiero entrar a discutir datos era un incremento muy importante respecto del cero coma setenta y ocho que se había producido

la realidad es que cada vez hay más hechos delictivos por lo tanto yo diría que la labor policial no es lo suficientemente eficaz salvo que el objetivo de su gobierno sea que se incrementen los delitos que lo dudo mucho no se consiguen los objetivos que se buscan algo está fallando

y vamos a analizar otro rato que es el número de personas inculpados por cada uno de esos hechos delictivos

sí ha mejorado el dato de dos mil dieciocho

entre el diecisiete y el dieciséis más de un seis por ciento en este último periodo

eso nos lleva a un dato definitivo señora consejera en torno a tres de cada diez delitos de los que tiene conocimiento la policía son finalmente resueltos porque se ha encontrado y se ha inculpado a las personas necesarias y se han tramitados esos expedientes para que sea la justicia quien decida qué es lo que ha pasado

penal que es su función el dato concreto ha bajado de treinta y uno coma tres treinta y uno coma tres por ciento

que no es correcta o al menos es mejorable pero yo hoy señora consejera como no quiero que se enfade conmigo no vengo a criticar su gestión yo vengo a hacerle propuestas concretas para eso

personas cercanas a este ámbito policial para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo y cómo se podría mejorar los representantes sindicales y usted tiene hoy los titulares

los sindicatos policiales le piden que se mejore y se amplíe la formación de los propios

formación general formación general de los agentes la formación básica la actualización de esa formación básica no puede ser

un caso concreto y que es exagerado la realidad es la mitad son cuatro o cinco años el periodo que pasa entre un ejercicio de tiro y

si usted encendiera su teléfono móvil cada cuatro o cinco años o incluso

pues todos sabemos que no y esa situación hay que mejorarla y por lo tanto la formación incluso la del tiro

se les exige que hagan prácticas de tiro exámenes

los agentes de la policía autónoma no lo hacen más que de media cada cuatro años y eso no está bien esa formación hay que mejorarla el arma para los agentes que se dedican a la seguridad ciudadana a la prevención de delitos es un instrumento de trabajo es un instrumento fundamental que es mejor no usarla

la integridad física y la vida de los propios agentes o de los ciudadanos lógicamente tienen que estar entrenados para hacerlo bien porque además no suelen ser las situaciones o las circunstancias más óptimas las que rodean cada uno de esos momentos y para evitar accidentes

práctica pero yo no me quería referir solamente a esa formación básica de esos aspectos básicos de la actividad policial sino que de cara a la persecución de los delitos digamos que los grupos o los equipos de investigación pues necesitarán algo que no tienen señora beltran de heredia que es la formación sobre delitos específicos es decir hay delitos que no son habituales los delitos los ciberdelitos

la integridad sexual de las personas los delitos contra la vida los delitos económicos los delitos medioambientales estos no ocurren todos los días no todos los agentes tienen que estar formados pero algunos

y la colaboración de esos agentes en la elaboración de los atestados diarios en la elaboración de la persecución del delito que hacen día a día en todas las comisarías que tenemos en euskadi tiene que

un especialista en ciberdelitos en cada una de las comisarias en cada uno de los turnos por si ocurre algo pero bueno sí la interconexión entre unos agentes y otros para que

instrumento policial que es el atestado policial que es el que facilita la persecución del delito pues sean más inmediata y todos sabemos que eso no funciona y que esa formación no es la más correcta pero eso ya no solamente nos lo dicen los agentes que forman parte de la representación sindical

desde el mundo de la justicia que son quienes reciben esa información para la persecución de los delitos y así

qué podíamos proponer de este parlamento para mejorar la gestión de la del enjuiciamiento de los delitos y la averiguación y castigo de los delitos

para que la elaboración de los atestados fuera más dirigida a lo que tiene que ser la investigación policial para

condenatoria cuando se ha cometido el hecho delictivo y sobre todo la mejora en los medios materiales que tienen los agentes

que en el siglo veintiuno sigamos a pesar de que tenemos una ley de enjuiciamiento

décimonónica no podemos pretender que nuestra policía funcione como en el siglo diecinueve

rodearse de muros y cerrarnos al mundo exterior para proteger nuestras esencias

eficaz eficiente que esté abierta que esté conectada con el mundo con otras policías con otros servicios con los servicios de justicia de la misma manera que dentro de los servicios de justicia las cosas no funcionan es decir ya sabemos

a los miembros del instituto vasco de medicina legal pero que no estén ni siquiera conectados dentro de su propio departamento

que faciliten el enjuiciamiento rápido de los delitos eso es también décimonónico no puede ser señora consejera de justicia esas cosas hay que mejorarlas yo por eso le pregunto cuestiones tan sencillas como la formación específica

llenan el día a día las comisarías vascas y los juzgados de instrucción vascos señora consejera cómo va a mejorar esa formación

qué proyectos tiene o qué va a poner en marcha este próximo dos mil veinte para mejorar esa situación que se le reivindica desde el mundo de la justicia desde este parlamento y desde

y en cuanto a los aplicativos informáticos hay algún plan hay algún algo pensado

nosotros desde aquí señora consejera quiero decir no es tan difícil

y que esté interconectado con el resto de las administraciones vascas
estoy deseoso de oír su opinión muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

y voy a empezar por el final es la piedra angular de los objetivos de la ertzaintza en la

si insistimos como habitualmente lo hacemos si insistimos en que los ciudadanos las ciudadanas denuncien todos los hechos si insistimos en esa

precisamente por eso porque el objetivo final de la ertzaintza es

las denuncias que se presentan en nuestras comisarías en las oficinas de atención ciudadana o bien aquellas que se realizan de oficio o bien aquellas otras que son encargadas directamente por la judicatura por la propia fiscalía yo

importante que tenemos cosas que mejorar porque sería innecesariamente pretencioso por mi parte que me negara a mejorar aquellos

que forman parte del amplio abanico de las funciones que conlleva una investigación policial pero evidentemente evidentemente y después de leer

no nos debe llevar a construir la casa por el tejado de las carencias al contrario creo que primero hay que saber reconocer aquello por lo que somos reconocibles

demandan de nuestros servicios y en este caso las personas que se ven afectadas por las consecuencias de la comisión de algún delito y lo denuncian y porque es ese el compromiso que tenemos con la sociedad vasca el compromiso y el deber de investigar

detener a las personas infractoras y ponerlas a disposición de la justicia y ponerlas a disposición de la justicia también con las pruebas suficientes para que la justicia pueda hacer su trabajo ese es el compromiso que tenemos actuar con eficacia y con eficiencia las dos cosas eficacia y eficiencia lo ha dicho y con la

nada es para siempre que las actividades hay que evaluarlas hay que medirlas y si es preciso también modificarlas y para eso también está la evaluación social una parte importante cómo nos evalúa la sociedad y precisamente ayer conocíamos los datos del sociómetro y

qué tres problemas o preocupaciones principales tiene en su vida diaria

están muy alejadas de sus preocupaciones más relevantes el dato que nos daba es que el cuatro por ciento de la ciudadanía vasca señala la inseguridad

le afecte de una forma especial o que sea su principal problema incluso la percepción

en unos parámetros estables desde dos mil doce trece catorce siempre por debajo del catorce por ciento veíamos ayer la cifra del

euskadi tres de cada cuatro ciudadanos o ciudadanas tres de cada cuatro dicen que

funciona entre bien y muy bien la valoración por tanto es altamente positiva nos coloca detrás de los servicios de salud y

datos desde luego que no corroboran en absoluto esa interpretación que usted hace en cuanto a los servicios policiales y a los servicios de la

percepción que usted quiere trasladarnos aquí por eso respondiendo a su pregunta cuál es mi propósito y cuál es el propósito del departamento cuál es el propósito de la ertzaintza en relación con la protección de los derechos

ser eficaces mire le voy a dar algunos datos

de este año por citar la estadística más reciente la ertzaintza lleva registradas sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro denuncias el cincuenta por ciento son infracciones penales

entre hurtos robos de carteras móviles fundamentalmente y estafas por

son bueno casos de infracciones muy leves y no le resto importancia a la infracción estamos hablando de delitos estratégicos de aquellos delitos que todas las policías europeas consideran como estratégicos también por la alarma social que generan

es de las más satisfactorias y equiparables a las regiones más seguras de europa en lo que va de año se han resuelto el cien por ciento de los homicidios los nueve

la tasa de resolución de las agresiones sexuales más graves ha sido del noventa y cuatro por ciento y el sesenta y seis por ciento están resueltos todos aquellos delitos

las tasas de resolución responden también a un hecho que en el mismo periodo le voy a dar el dato la ertzaintza ha inculpado a veintiuno mil seiscientos diecinueve personas y estos son datos que satisfactorios son datos positivos y son datos de investigación y resolución de los casos ya sé que son mejorables no lo pongo en duda y además

pero creo que estos datos que acabo de darle

que hay una experiencia que hay unas prácticas de trabajo consolidado donde la calidad de los registros la trazabilidad de las denuncias la solidez de los atestados son una preocupación constante de mejora en la ertzaintza y en el propio departamento y desde luego las decisiones que se van adoptando son decisiones absolutamente fundamentadas

ya estamos trabajando seguimos trabajando para ser más eficientes para ser más eficaces para seguir protegiendo los derechos de la ciudadanía y perseguir estos delitos y lo hacemos porque fundamentalmente el modelo

está orientado a resultados a valorar resultados y no hay resultados si no hay investigación en la

uno de cada cuatro agentes está dedicado a investigación a funciones de policía

uno de cada cuatro uno de cada agentes también hay otros indicadores que nos sitúan en parámetros de investigación que son homologables a las policías de nuestro entorno somos la comunidad de todo el estado que más diligencias práctica por vía de urgencia en la que más juicios rápidos se celebran en dos mil dieciocho las diligencias por vía de urgencia fueron seis mil novecientos diez en torno

esto supone que estamos siete puntos por encima de la media estatal y esto supone también que pone en valor la virtualidad de estos procedimientos de urgencia como respuesta

ante esas formas delictivas más frecuentes sobre todo infracciones penales leves que tienen que ver con hurtos y delitos menores esto también es un indicativo de

fiscal en la comparecencia que tuvo aquí en el parlamento es una de las palancas impulsoras de que esto sea así de que cada vez haya más juicios rápidos y esto como le digo evidentemente es mérito de la organización

sobre todo también es mérito porque trabajamos en una relación constante y comprometida con las autoridades judiciales y en especial con las fiscalías entre otras cuestiones también para ir mejorando en los atestados con criterios compartidos como

formación continua una organización adecuada de los servicios experiencia acumulada colaboración ciudadana relación fluida también con los órganos judiciales compromisos sobre todo compromisos con el servicio público que debemos a la ciudadanía

son elementos que contribuyen a responder con solvencia a las demandas de seguridad ciudadana la observación de esta realidad solamente desde la mirilla sindical o de intereses más o menos partidistas desde luego no cambia la realidad la realidad es la que es y la percepción que tiene la ciudadanía del trabajo que hace la ertzaintza también y el sociómetro acaba de recordarnos que la sociedad vasca tiene una percepción una valoración positiva y una percepción más que positiva

línea continuaremos trabajando como le he dicho mejorando todo aquello que veamos que es posible mejorarlo
desde luego midiéndonos cada día en base a los resultados eskerrik asko

labores policiales y de investigación y persecución de los delitos que existen

muy mejorable como todo en esta vida y que eso es a lo que tendremos que llegar

lo que había dicho usted aunque no me ha puesto instrumentos concretos encima de la mesa de lo que va a hacer a partir de ahora pero ha terminado fatal señora consejera

los representantes sindicales por un lado y la fiscalía del tribunal superior de justicia por el otro y usted me ha dicho que no se pueden ver las cosas

institucional por su parte señora consejera claro que tenemos una tasa de enjuiciamiento de delitos rápidos mucho más alta que en otros sitios pero es que igual eso no es un problema de la ertzaintza o una satisfacción que debemos agradecer a la ertzaintza

señoría mire usted yo empecé a ejercer el derecho en el siglo pasado a finales del siglo pasado

igual que hoy y mire usted que la tecnología ha avanzado de entonces a ahora los atestados se siguen haciendo en papel para enviar a los juzgados eso es décimonónico pacato vergonzoso antiguo

una pérdida de medios es insostenible ecológicamente y sobre todo es una pérdida de medios

el aplicativo informático es una porquería todos los agentes protestan de lo mal que funciona que no permite sacar la estadística de delitos en condiciones porque no se puede rellenar mientras se está haciendo el atestado policial concreto en ese momento determinado atestado que hay que pasarlo a papel para echar la firma y unirle

y agentes dedicados o que podrían dedicarse a otras funciones se cogen los atestados debajo del brazo desde la comisaria y los llevan al palacio de justicia y hacen cola

es eficacia policial eso es una vergüenza señora consejera eso es una vergüenza y eso es lo que yo le estoy pidiendo que mejore es un aplicativo informático que es sencillísimo

para poder hacer ese tipo de cosas señora consejera no le pedimos más facilitaría la labor de los agentes facilitaría la labor de los juzgados porque cuando ese atestado llega en papel hay que desgraparlo

para las abogados para las defensas para las acusaciones

para el instituto vasco de medicina legal y venga papel y venga papel y venga papel por qué porque no les da la gana hacer funcionar un expediente electrónico un expediente electrónico

no funciona al cien por ciento y en este caso la culpa no es de la señora san josé es de su departamento porque ellos ya tienen los medios preparados para recibir ese tipo de información ese tipo de información que facilitaría muchísimo el enjuiciamiento rápido de los delitos y eso significaría que los culpables empezarían a pagar antes los procedimientos no se dilatarían

no perderían tiempo en investigaciones que se habrían podido cerrar en los juzgados de guardia señoría eso es lo que nosotros le pedimos eficacia y eficiencia en la labor policial y por eso señoría le insisto forme a los agentes que se lo están pidiendo a gritos y mejore los aplicativos informáticos que son necesarios va usted hacer algo en esos dos

muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna beltran de heredia andrea

presentación de los presupuestos y estaría encantada de que los apoye para poder llevar a cabo

en relación me hablaba usted de la formación forme usted a los agentes mire materia de formación cuatrocientos sesenta y dos agentes ciento treinta y dos mujeres y trescientos treinta se han formado en trece cursos de especialización en investigación criminal que han ido integrando

cada curso tiene trescientos horas y además una obligación de permanencia mínima de ocho años es decir que son agentes que van integrando los grupos de investigación

la investigación se integra a tres niveles como usted

seis grupos de especialización de grupos especializados en delitos informáticos económicos medioambientales crimen organizado delitos contra las personas investigación de accidentes el segundo nivel que lo constituyen los servicios territoriales de investigación más orientados a la investigación del crimen organizado y además están los servicios de investigación local comisaría por comisaría eso es lo importante más allá del papel usted ha utilizado los cinco minutos para hablar del papel

envuelven a la necesidad de poner la firma encima del papel en esta estructura actual esta es la estructura actual de los servicios de investigación más actividad que nunca también por parte de los grupos de

más recogida de evidencias por tanto mejor elaborados los atestados con más pruebas una estructura además que confluye con los servicios de inteligencia

trabajamos en un trasvase continuo de información entre investigación e inteligencia dos pilares fundamentales en la organización de la

uno de cada cuatro agentes de la ertzaintza está integrado

inteligencia en la actualidad todos todos los alumnos y alumnas que se están formando en la academia reciben instrucción específica sobre la recogida de denuncias la redacción de informes la elaboración de los atestados sin que para ello tengan que acreditar un curso

reforzar el área de investigación y no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo esto nos permite también destinar más recursos a la investigación de casos tratamos de adecuar el trabajo el trabajo que realizamos a las prácticas de los entornos policiales que más paralelismos tienen con el nuestro con nuestro modelo un modelo de despliegue amplio un modelo bueno con una implicación social importante

y los servicios de investigación criminal en particular o de inteligencia con los órganos judiciales

con relación a la inclusión telemática de los atestados policiales en la plataforma digital justizia bat en el departamento de seguridad

estamos preparados y estamos a la espera de la

batera un paso que es imprescindible para la posterior incorporación telemática de los atestados al sistema informático de la administración de justicia

lo he dicho antes nuestra colaboración con los órganos judiciales se concreta en una participación sistemática en la comisión nacional de coordinación de policía judicial en el comité técnico de empresas perdón en el comité técnico asesor así como en el servicio ejecutivo de blanqueo de capitales el sepblac en el centro

de policía judicial participación que también conlleva formación formación e información para mejorar las investigaciones y para mejorar los resultados y para finalizar

relación con los órganos judiciales le tengo que decir que desde la academia vasca de policía y emergencias precisamente

investigación criminal como en lo que es la formación transversal en los cursos de acceso se cuenta con la judicatura y con la fiscalía
se cuenta para que den formación específica a nuestros agentes eskerrik asko eskerrik asko beltran de heredia andrea

consejeras consejero señorías buenos días el pleno del parlamento vasco hace

en sesión celebrada precisamente el diecisiete de octubre aprobó y tuvo un acuerdo unánime en relación con la economía social y el plan estratégico

positivamente por el desarrollo de la economía social por el protagonismo de la economía social y sus efectos en los trabajos de este parlamento tenemos que recordar la sesión monográfica de la comisión de trabajo donde se

modalidades el país vasco fue sede del foro global mundial de la economía social dos mil dieciocho donde se hablaron de la potenciación de esas formas de economía de una manera

de la ley de cooperativas de euskadi una ley de cooperativas positiva

y que será un referente seguramente en relación con lo que es la normativa de economía social en este caso de las cooperativas en nuestro ámbito pero bueno lo será como referente fundamental la moción que aprobamos por acuerdo unánime decía

de economía social de carácter interdepartamental implementando los recursos económicos necesarios para su desarrollo todo ello para el impulso de la economía social un plan estratégico para la economía social eso es algo importante y hemos aprobado eso en este parlamento también estamos en el

el departamento habrá empezado a trabajar en la implementación de medidas de elaboración de cuestiones en ese plan estratégico y eso es lo que queremos que nos responda qué nos explica de ese camino es importante tomarse ese camino

es de la relación positiva que se ha dado entre el legislativo y el ejecutivo respecto a la economía social en euskadi debo reconocer que usted ha sido uno de los agentes más activos en esta empresa

la constatamos desde la primera intervención para dar a conocer las líneas estratégicas sobre las que iba a transcurrir nuestro mandato

junto a las iniciativas de impulso que como ha dicho usted han aprobado y han dado como resultado una fotografía plenamente positiva cuando estamos ya

la propuesta presupuestaria que les estamos haciendo en estos momentos es de un cincuenta y seis por ciento superior a la que había en la pasada legislatura es decir en dos mil dieciséis

constatado la necesidad de realizar una reflexión a fondo de la situación y proyección de la economía social en euskadi

no incluye a todo el abanico de la economía social pero sí es una realidad que operan sobre la parte más importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo como bien ha dicho

de octubre ustedes aprobaron una proposición no de ley en la que entre otras cosas nos instaban a elaborar un plan estratégico de economía social de carácter interdepartamental

actividad cotidiana en el mes y medio escaso desde que ustedes aprobaron aquella iniciativa el departamento de trabajo y justicia a través de la dirección de economía social nos hemos centrado en dos ejes de actuación continuar con los trabajos que ya habíamos

para fomentar y reforzar la economía social y planificar las actuaciones

de economía social en los términos en los que ustedes lo aprobaron señoría la presentación del plan de la dirección de economía social como comunicación en comparecencia mía ante esta cámara con las cincuenta y ocho

y reflexión que nos hemos propuesto en realidad su mandato nos obliga a dar un paso más y trascender al ámbito de nuestras competencias para coordinarnos con otros departamentos y estamentos de la sociedad civil el ámbito de la economía social es muy amplio

el departamento de empleo y políticas sociales tiene competencias sobre un pilar fundamental como son las empresas de inserción y los centros especiales de empleo

gobernanza pública y autogobierno se ocupa de fundaciones y asociaciones

hacienda y economía de las entidades de previsión social estamos manteniendo contactos para integrar todos estos departamentos a todos estos departamentos junto con instancias

universidades expertos etcétera en la elaboración de este plan estratégico eskerrik asko san josé andrea

gracias presidenta sí gracias señora consejera por la respuesta le agradezco

la confección y la redacción de ese plan estratégico efectivamente

una estrategia en economía social qué metas tiene que tener y qué va a conseguir es decir va a conseguir creación de empleo lo fundamental y lo primero porque eso es así va aparejado el estímulo a esa forma de economía siempre da creación de empleo

y además son fórmulas de creación de más empresas porque son muchas las empresas

y además es desarrollo de planes económicos en zonas

instalados sino en zonas rurales en pueblos de nuestra geografía

de empresas de economía social era tan importante que la moción dijese lo del plan interinstitucional está bien claro usted lo ha repetido

asociaciones y fundaciones con labor económica mutuas mutualidades cofradías de pescadores sociedades agrarias de transformación es una cuestión muy importante y mire

en otros sitios del pacto sobre la economía social y de sus formas de funcionar y además lo que ha dado

hay un pacto sobre la economía social en murcia no les vamos a enseñar nada nosotros

está hecho para que acabe en dos mil veinte donde hay

a través de lo que es la articulación de ese pacto esperemos que el nuestro no sé cuánto cuantificará pero

san josé andrea zurea da hitza sí señor barrio coincidimos plenamente
en que la economía social crea empleo crea empleo de calidad y bueno nuestros pasos van a transcurrir en la misma

por ponerle un ejemplo pues no dispongo de mucho tiempo hace apenas diez días mantuvimos una reunión con todas las familias de la economía social con las tres universidades del país vasco y la presencia del señor

de investigación en economía de la unión europea en esta reunión tuvimos la ocasión de exponer nuestro relato de la economía social enfocado a ese plan

de los representantes de la economía social universidades y valoración del representante de la unión europea vamos a continuar en esta línea y tenga la seguridad de que el trabajo